dagokio eta a estas alturas todos saben que el gobierno no ha cerrado algún acuerdo con ningún grupo parlamentario para la aprobación de las cuentas por lo que asume que hoy puede haber una devolución de las mismas y euskadi se quede sin presupuestos para el año diecinueve

como normal sería que ante la perspectiva hubiera antes de la celebración de esta sesión una retirada de las cuentas por parte del gobierno evitando así un revés parlamentario que minase al ejecutivo

de ruido preelectoral pues bien este gobierno consciente de esta perspectiva ha preferido en este caso mantener el proyecto y asumir la visualización de este revés

presentado y con las mejoras que pueden producirse en su capacidad

y de ello se debe enterar la propia ciudadanía y en segundo lugar porque cree como gobierno que deben de explicarse las razones que han conducido a esta situación

han hecho para llegar a este escenario el gobierno no está repartiendo responsabilidades ni mucho menos sabe que es a él a quien le corresponde en minoría parlamentaria los acuerdos necesarios para poder sacar adelante estas cuentas y que es el responsable máximo de ello pero este es un proyecto de ley

y por ello es en el parlamento donde se deben dar las explicaciones debidas y no solo en los medios de comunicación

hasta ahora es evidente que esta ley no es una ley cualquiera sino que es una ley que se proyecta al resto de la legislatura tanto para el gobierno como en gran medida también para la oposición

ante la misma ya que habrá que explicar su posicionamiento tanto político como de otra índole con razones entendibles desde lo económico y no solo por razones

en el mero desgaste político sin ser capaz en ningún momento

económica y política del proyecto planteado por el ejecutivo

terminar la sesión de hoy y antes de dar a conocer el contenido pormenorizado de las negociaciones con los grupos de la oposición en esta cámara aun sin garantías

es procedente abordar el contexto económico que vive euskadi el marco presupuestario que se ha tenido en cuenta para priorizar las políticas públicas a desarrollar en dos mil diecinueve y comentar algunas cuestiones que estando reservadas a la ley puede aún formar parte del texto articulado

que viene que tuvo lugar el pasado seis de noviembre para el resto de este plenario sin embargo será

y de la programación presupuestaria batzordean egin nuen agerketan adierazi nuenez

de los dos últimos años una contaste la elevación de las previsiones de crecimiento

el avance del dato de crecimiento apunta una desaceleración algo más acusada de la prevista no es tan importante el diferencial de una décima del dos coma seis

hacia una senda de crecimiento más baja y el hecho de que parece que el crecimiento se situará en torno a las tasas del dos coma ocho este año y del dos coma tres por ciento el año que viene nos encaminamos pues hacia una nueva senda algo por encima del dos por ciento a pesar del menor crecimiento la previsión de creación

como ya se anticipó en el uno coma cuatro por ciento para el dos mil diecinueve

puestos de trabajo nuevos habiéndose recuperado de esta forma casi ochenta mil puestos de trabajo equivalentes desde el mínimo de dos mil catorce pero faltando aún más de cuarenta y ocho mil para volver al máximo de dos mil ocho

primera desplegar medidas que influyan sobre la productividad a través de la innovación la inversión y el capital humano segundo continuar con la recuperación

que además son parte esencial de la calidad de los servicios públicos y tercero seguir progresando en la consolidación fiscal para estar preparados para el futuro en segundo lugar quisiera hacer referencia al marco económico presupuestario en el que se sitúa el presente proyecto de las cuentas públicas

de las relaciones financieras con el estado y una vez descontado el efecto de la regularización

con doscientos sesenta y seis millónes menos de endeudamiento de lo previsto este año esperamos consolidar aquel avance y cerrar el déficit y por tanto con trescientos millónes menos de emisión alta

y eso después de incorporar una inyección de inversiones al presupuesto de cincuenta y cuatro coma cuatro millónes de euros gracias al superávit de nuestras cuentas del año diecisiete son estos antecedentes los que facilitan que el presupuesto para el año diecinueve se pueda presentar equilibrado en su cuenta financiera y frente a quienes pretender por ejemplo

e incluso elevar todavía más el gasto manteniendo el déficit público debo advertir que eso sencillamente no es posible porque

las reglas de estabilidad y yo diría que tampoco es conveniente retrasar la consolidación fiscal y no digamos ya financiar nuevo gasto recurrente con ese déficit como a veces se sugiere aunque creemos que se debería flexibilizar la aplicación de la regla de gasto

financieramente sostenibles de este año o estableciendo unos valores más elevados de la tasa de referencia no se puede incumplir postulando incrementos de gasto del doble

dos mil diecinueve y además contamos con la ventaja de que debido al incremento permanente de recaudación

tenemos cien millónes de euros para gastar adicionalmente

una rápida visión de las principales características se prevén unas aportaciones de las diputaciones forales por importe de diez mil ciento cincuenta y cinco coma uno millónes de euros

de seiscientos treinta y uno coma siete millónes de euros pero que es de trescientos diecinueve sobre el cierre previsto por el consejo vasco de finanzas publicas para este año que asciende a nueve mil ochocientos treinta y seis millónes

por tanto hoy tenemos un proyecto de presupuestos que alcanza los once mil setecientos ochenta y cuatro millónes

pero un aumento real del tres coma seis por ciento cuando se prescinde de los pasivos financieros y de la encomienda de gestión

en equilibrio con un superávit de cinco millónes de euros y con un endeudamiento neto de ciento sesenta y cinco coma cuatro

la amortización asciende a mil noventa y ocho coma tres millónes de euros y el endeudamiento total se situará en nueve mil ciento treinta y cuatro coma dos millónes de euros

cerrar el diecinueve con un nivel de deuda del trece coma dos por ciento

así pues tanto en términos de déficit como de deuda nos situamos por debajo de los límites pactados que a día de hoy son

el capítulo más importante del presupuesto es el relativo a los gastos de personal que en términos consolidados absorbe el cuarenta y tres por ciento del gasto real como consecuencia de los importantes acuerdos en materia educativa seguridad o carrera profesional de osakidetza de la subida del dos coma veinticinco por ciento

este capítulo presenta un incremento del cuatro coma nueve por ciento este dato da cuenta del gran esfuerzo que vamos a realizar en materia de personal y nuestro compromiso con la recuperación salarial asimismo quiero destacar el impulso de la inversión con un crecimiento del siete coma cuatro por ciento en la inversión de gestión propia

las dotaciones para el plan de ciencia tecnología e innovación ascienden a cuatrocientos sesenta y uno coma cinco millónes de euros y su crecimiento alcanza una tasa del seis coma cinco por ciento claramente por encima del cinco por ciento

finalmente el último de los rasgos que quisiera destacar tiene que ver con las políticas sociales no cabe duda de que el peso del gasto social tiene un carácter estructural pero el setenta y ocho por ciento de que alcance en este proyecto de decisiones importantes al respecto tras

debe apuntarse lo siguiente salud es el departamento que cuenta con mayor presupuesto

y un aumento de ciento veintidós coma ocho millónes educación

de ciento veintidós coma seis millónes que supone un aumento del cuatro coma cinco por ciento

mil veintiocho coma ocho millónes ya que la renta de garantía experimenta una actualización del dos coma veinticinco por ciento en el proyecto

a la que crecen los salarios sin prejuicio de que este incremento pudiera ser mayor al alcanzarse un acuerdo presupuestario igualmente también podría ser mayor

ha experimentado un incremento de treinta y cuatro coma uno respecto a dos mil dieciocho los créditos de gestión de ley vasca de la variante sur ferroviaria en el año diecinueve contarán con ciento tres coma cuatro millónes de euros

doscientos sesenta millónes medio ambiente planificación territorial y vivienda que es el departamento que más crece un ocho coma cuatro por ciento contará con doscientos veintitrés coma cinco millónes trabajo y justicia doscientos diecisiete coma cuatro

gobernanza pública experimenta una subida de dos coma cinco millónes y su presupuesto es de ciento veintiuno millónes

que incrementa su presupuesto hasta los cuarenta y uno coma dos millónes desde la perspectiva de la clasificación económica el importe del

al servicio de la administración en un dos coma veinticinco por ciento así como el impacto de los distintos acuerdos en materia educativa seguridad o carrera profesional de osakidetza y además se consolida la aportación

itzarri que podrá llevarse hasta el uno coma cinco por ciento de las dotaciones para gasto de personal del ejercicio por acuerdo del consejo de gobierno

del gasto presenta un volumen que son las transferencias y subvenciones un volumen de tres mil quinientos sesenta y cuatro millónes de euros una cifra similar a los tres mil seiscientos diecisiete que conforman el capítulo segundo que es donde se incluye el contrato programa de

estos presentan doscientos treinta y tres coma tres millónes la misma cantidad que en el presupuesto del año

no voy a adentrarme en las modificaciones del texto articulado porque no me daría tiempo en esta intervención

estratégica a través de su inserción en un horizonte a medio plazo y su vinculación a los objetivos y desde los principales planes estratégicos y departamentales redactados y previstos para la legislatura

de crecimiento sostenido y de consolidación fiscal adecuados

y marco presupuestario en positivo como si fuera a haber cuentas para el año dos mil diecinueve en realidad

puesto en condicional en hipotético porque puede que ello no se materialice el avance se puede quedar en frenazo o incluso en retroceso en muchos frentes económicos veámoslo ahora en negativo y preguntémonos qué no se haría que se perdería y qué se retrasaría por falta de las cuentas el año entrante lo formularé muy telegráficamente

inversiones del siete coma cuatro por ciento en salud infraestructuras y vivienda estamos hablando como inversiones en los centros de salud ordizia y aretxabaleta estamos hablando como plan de choque de zonas desfavorecidas en ezkerraldea como la lonja

de la ampliación del tranvía de atxuri bolueta estamos hablando en vivienda

para llevar a cabo las actuaciones pactadas en los acuerdos de personal ni las obras previstas en las haurreskolak etcétera yo creo que habría una serie de impactos

presupuesto también en la materia de la subida salarial

cuando se inicie el ejercicio bien y ello solo por citar algunas de las cuestiones algunas de las implicaciones negativas que

sé que pueden pensar que incluso sin ley se pueden acometer muchas de ellas si lo quiere el gobierno digo esto porque hace días un líder de un grupo de la oposición comentó frívolamente en una radio que la subida salarial de los funcionarios por ejemplo se podía hacer por decreto por parte del gobierno pues bien ni eso es así

tendrían créditos para ser abordadas ni qué decir tiene que la subida de la renta de garantía de ingresos

no podrían llevarse a cabo pero tampoco la mayoría de los programas subvencionales voy terminando ya

de cómo ha llegado el gobierno a este pleno sin ninguna garantía de sacar adelante las cuentas cuál ha sido el camino recorrido y las impresiones recibidas de sus conversaciones con los grupos de la oposición y por qué lo que sin duda

como la crónica de un fracaso este gobierno lo vive como algo posible

y bastante antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno vasco hemos brindado la oportunidad de poder escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios de cara a fijar prioridades

que existía un margen significativo para la realización de inversiones les hemos dado cuenta del marco presupuestario de una manera

ya el día seis de noviembre fecha de la presentación en comisión del proyecto aprobado por el gobierno

de uno de los grupos no había llegado a tiempo para su consideración antes de la aprobación presupuestaria una segunda correspondiente a otro grupo parlamentario era tan desmedida

y cómo se formó del tercer grupo no habíamos recibido nada ya que de momento no había entrado en el debate presupuestario alegando razones

hoy sin embargo podemos decir que en pos del acuerdo el gobierno se ha reunido con los tres grupos parlamentarios de la oposición en reiteradas ocasiones desde mediados de noviembre desgraciadamente poco ha habido que hablar con dos de los grupos ya que tras constatar

ideológica y postulados económicos han optado por abandonar las conversaciones que el partido popular ha sido el más claro en su prevención al acuerdo es una constatación de hemeroteca siempre fue claro al no querer acercarse al proyecto y poner como condición el alejamiento

ciertamente sabedor del no por anticipado y con seguramente otras razones reales para un alejamiento de las cuentas vascas y de este gobierno ha dejado por explicar un no a unas cuentas que garantizan una visión compartida

de estabilidad presupuestaria disciplina en el ingreso y que en cierto modo resultan una lógica evolución

de las que se aprobó el año pasado pero esta postura política

con elkarrekin podemos no han podido llevarse a cabo seguimos pensando que la estratosfera no es un buen sitio para negociar

y así se les hizo saber los principios de realismo político al que se juega en otros territorios por parte de los correligionarios de esta coalición en euskadi deberían ir imponiéndose para un acercamiento económico financiero y presupuestario que contenga de negociaciones

entre el gobierno y elkarrekin podemos este gobierno siempre ha sido consciente de que la aprobación presupuestaria

y es ingenuo pensar que solo una visión económica va a ser pero también es innegable que son decisiones financieras realistas responsables

solo esas caben en una negociación presupuestaria combinar estos elementos con una visión política ha sido nuestra tarea como ya advertimos en la presentación de las cuentas para el año dos mil diecinueve

política dijimos que buscaríamos un acuerdo con quien realmente tuviera voluntad de negociar y quisiera acordar mejoras sociales y políticas sociales razonables sin entrar en aventuras económicas insostenibles que hipotecasen

ni la igualdad social necesaria para la cohesión general y así lo hemos hecho con eh bildu

que desgraciadamente a día de hoy no ha dado fruto es por todo ello el caso más sorprendente porque a pesar de haber en apariencia voluntad

contra las dilaciones y la falta de respuesta concreta a las sucesivas ofertas del gobierno mejoradas unilateralmente flexibilizando sus posturas unas ofertas que entendíamos suficientes y muy presentables algo razonable y digno para ambas partes

que eran capitales para eh bildu su propuesta inicial partía de un escenario económico claramente equivocado en el que por cierto a día de hoy persisten

y empleo dicho de otro modo estaban dispuestos a no tocar nada del presupuesto sino a mejorar esas dos políticas concretas

que solo quería fijar su mirada en los colectivos de pensionistas y en su situación económica manteniendo que ello se puede hacer en euskadi a través

o lo que es lo mismo a través de la renta de garantía de ingresos

claramente sectaria respecto a los perceptores generales de la renta de garantía de ingresos y que eh bildu sabe insostenible

no se dice cómo ha de hacerse hasta que se concretan las enmiendas de la coalición donde se establecen unos parámetros de gasto y de cuantías y condiciones de acceso a la renta de garantía

que desbordan los márgenes de la responsabilidad pública en euskadi sin embargo se continua negociando hasta el día de ayer en el que el gobierno

da a conocer públicamente su oferta cuasi definitiva que es a la que habíamos ido avanzando las dos partes a falta de que interpretemos como flecos de negociación

semanas de negociación no puede enfrentarse a un debate de totalidad en abierto y así lo habíamos comentado con la coalición

un plano eminentemente económico y otro plano más gestor en lo económico se ha ofrecido elevar en dos mil diecinueve tres coma cinco puntos el importe de la rgi sobre el vigente del año dos mil dieciocho y otro tanto

este porcentaje alcanzaría el siete por ciento en el año dos mil diecinueve

pensionistas y del cinco por ciento para este colectivo el año dos mil veinte en el plano gestor

importantes uno garantizar la existencia de una unidad específica en lanbide para gestionar las ayudas a estas personas con un modelo exclusivo

de atención y segundo la elaboración en un plazo de seis meses de un informe que analice dentro de las unidades beneficiarias de la renta de garantía de ingresos

las distintas situaciones personales y los estados de necesidad a ella asociados

las mujeres en situación de vulnerabilidad económica a los efectos de proyectar posibles abordamientos de estas situaciones individualizables en el derecho

en el marco de las discusiones que se den para la modificación de la regulación de la normativa de garantía de ingresos o la presupuestaria que resulte de aplicación y tercero una campaña informativa para dar a conocer las medidas anteriormente citadas

complementaría los compromisos en esta materia en lo que hace al empleo se ha ofrecido un incremento en el gasto dedicado a esta política que puede llegar a los cuarenta y cinco millónes de euros este ejercicio entre créditos de pago y créditos de compromiso

de calidad para jóvenes el relevo generacional y ayudas a parados de larga duración todo ello a través de la reelaboración

o la creación de nuevos programas con la participación de eh bildu en su diseño e implantación con otros protagonistas que se unirán a los empleadores actuales

o el autoempleo además se había ofrecido extender el acuerdo a otros extremos de no menor importancia tales como la recuperación de las minoraciones habidas desde el año dos mil doce en algunas políticas

o el compromiso de llevar a delante de manera consensuada algunas inversiones sostenibles si las disponibilidades y los remanentes lo permiten como así parece ser

a una oferta de gobierno a nuestro entender tan generosa y digna ha sido la de regresar

a su propuesta original explicada en enmiendas

como si casi nada se hubiera negociado y como si la oferta hecha pública por el gobierno

que nunca quisieron apoyar los presupuestos y que han estado engañando al gobierno y lo que es peor

la sensación de que se ha abusado de la paciencia del gobierno que siempre ha actuado con lealtad comunicativa exquisito en las formas y claro en los contenidos es que queda

rechazar la oferta gubernamental por cicatera y lejana a sus pretensiones tampoco le sitúa en una buena situación y les hace en cierto modo corresponsables del nulo avance conseguido

eh bildu sabe que el gobierno vasco no puede ni debe hacer política de pensiones sabe que solo a través de instrumentos de inclusión

acceder a mejorar las condiciones económicas de los pensionistas más necesitados

incluso sin su concurso porque no en vano el propio proyecto presupuestario remitido a la cámara incrementa de manera importante la cuantía de la renta de garantía de ingresos ahora bien

de pensionistas haciendo políticas directas de pensiones es un brindis al sol en lo económico una injusticia para muchos colectivos que requieren

es usar el dinero de la ciudadanía vasca para pagar actuaciones que corresponde pagar a otro poniendo con ello además en peligro la propia política de renta de garantía de ingresos vasca me atrevo a decir que ni en el poder

lo que ahora está exigiendo para la aprobación presupuestaria y digo esto porque pide en euskadi desde la oposición lo que no es capaz de poner en práctica en navarra desde el gobierno

a pensionistas con necesidades y vulnerabilidad económica jaurlaritzak bere eskaintza mantentzen du

y porque eh bildu ha puesto en medio de la negociación dos materias concretas y un colectivo el de los pensionistas perceptores de la renta de garantía de ingresos también muy concreto

de alcanzar un acuerdo ha tenido que renunciar a destinar recursos a otras políticas y ha ofrecido a consensuar políticas de gestión que tienen un alcance más allá de lo estrictamente presupuestario ello también debe ser valorado

no obstante con su voluntad de poner sobre la mesa propuestas de mejora para el colectivo de pensionistas inviables económicamente improcedentes y peligrosas jurídicamente e injustas por discriminatorias para las políticas generales de la renta de garantía de ingresos pueden lograr subidas más que significativas y estas podrían quedar en nada que su incremento en un marco preanual y las mejoras en su gestión en el olvido presupuestario el gobierno está en clave de negociación real y leal pero visto el resultado cosechado hasta ahora es evidente

que el gobierno ha ido haciendo ofertas con sentido y viables y que las mantiene en idénticos términos y espero que dicha actitud

nadie lo entendería y yo personalmente creo que sería decepcionante y una desilusión que tras llegar hasta aquí podamos

como rehenes de su actuación haciéndoles creer que sabían

imposible como he venido repitiendo el gobierno mantiene su oferta

de ser aceptada por eh bildu ahora bien esta oferta solo puede mantenerse en el caso de que no haya una devolución del proyecto hoy

ya que llegar a dicho trámite sin un acuerdo presupuestario cerrado supone correr el riesgo de que el proyecto gubernamental se convierta en un proyecto de la oposición que perdería coherencia y su viabilidad real de ejecución el gobierno perdería el control sobre el presupuesto y entiendan que eso

queda tiempo para negociar y alcanzar un acuerdo pero el margen económico y el contenido es sobre el que hemos ofrecido en cualquier caso

en las condiciones que he expuesto pero con la misma contundencia debo decir no tiene miedo tampoco a un revés parlamentario de hecho está hoy aquí presentando un proyecto que sabe que puede ser hoy mismo devuelto e insisto no le tiene miedo a este revés porque ha actuado

y sin engaños y no puede pagar cualquier precio por coherencia institucional y por respeto a sí mismo el gobierno ha llegado a su máximo

está ofreciendo un acuerdo de ciento cuatro millónes de euros

para flexibilizar la unidad de convivencia en el colectivo de pensionistas con la debida prudencia está ofreciendo que dentro de trece meses

euros como mínimo es el punto de encuentro que si a eh bildu le parece poco debe inmediatamente votar sobre la devolución de las cuentas porque solo tiene veinticuatro horas para aceptar la propuesta no diez días

espero que por un mero cálculo político electoral eh bildu no pierda la oportunidad de comenzar a ser un partido útil para euskadi y sus gentes no obstante si ello se produjera hará todo lo posible el gobierno para llevar adelante las mejoras

de la negociación con eh bildu y lo hará de manera responsable a través de los instrumentos

de ninguno de los colectivos que no mejoran la situación con este no a los presupuestos

personas en riesgo de exclusión social jóvenes personas en situación de desempleo empresas que contratan con el sector público de euskadi etcétera

y hacia ellos va a estar orientada la ejecución presupuestaria

no he tenido la suerte de estar en la estratosfera nunca la verdad

los planteamientos del gobierno y los planteamientos de nuestra coalición estaban muy alejados en lo político y en lo económico esa es la razón no tiene nada que ver

izquierda unida con el conjunto de nuestra coalición elkarrekin vamos a defender hoy la enmienda a la totalidad que hemos presentado y vamos a rechazar los presupuestos del gobierno porque como venimos planteando

buscamos un cambio profundo en las políticas en euskadi rechazamos un modelo presupuestario que en nuestra opinión potencia el desarrollo desigual

un modelo que castiga a las y los trabajadores un modelo

contratas etcétera que además generan clientelismo e incluso corrupción

que renuncian a crear empleos de calidad limitándose a incentivar a través de subvenciones a las patronales la creación de empleos que siempre acaban siendo precarios y temporales por eso pensamos que es necesario plantear una alternativa desde la izquierda al modelo político y económico de este gobierno y pensamos que eso

al gobierno no pasa por aceptarles a ustedes los presupuestos a cambio de unos millónes pasa en nuestra opinión

hace un año decíamos que los presupuestos deberían ser una potente herramienta para repartir la riqueza e intentar alcanzar una sociedad

defendemos un modelo distinto no solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos públicos defendemos una actuación planificada de ingresos y gastos

es que en este país las rentas del capital cada vez ganan más y las rentas del trabajo cada vez pierden más y esta no es una afirmación baladí es un dato

como el consejo de relaciones laborales en euskadi

y las y los trabajadores cada vez pierden más estos presupuestos en nuestra opinión no están diseñados para cambiar esa realidad injusta al contrario están diseñados para mantener las cosas igual por eso desde la izquierda defendemos utilizar otras políticas presupuestarias para combatir esa injusta realidad económica mientras que los presupuestos proponen que se mantenga la situación igual y esa deriva inaceptable

trabajadora no es casual que la primera negativa del gobierno a nuestros planteamientos fuera la negativa a modificar la fiscalidad el consejero fue tajante a este respecto la fiscalidad acordada con el partido popular esa que nosotros describíamos como una fiscalidad al servicio de los beneficios del capital no se iba a modificar con la izquierda este año

que la fiscalidad acordada con el partido popular no se toca eso sí

anuncia futuras reformas fiscales para potenciar modelos de complementos privados a las pensiones un modelo que como saben nosotros no compartimos

son la evidencia clara de que el gobierno no está dispuesto a modificar sus políticas a lo sumo a aumentar algo el presupuesto pero con la misma lógica política de los años anteriores

una alternativa que pasa por unos presupuestos distintos para unas políticas distintas pasa por cambiar las prioridades pasa también por una distribución distinta de las partidas en todos los ámbitos educación empleo salud o protección social pasa por la red pública frente a la red concentrada por la prioridad de la atención primaria y la salud pública

o por los recursos para servicios públicos directo frente a tanta contrata y adjudicación a empresas privadas

porque planteamos la necesidad de una alternativa por la izquierda porque respaldar los presupuestos del gobierno a cambio de algunos millónes pero sin modificar la estructura y prioridades de los mismos

que no garantizan una más justa redistribución de la riqueza por eso hoy los parlamentarios de ezker anitza y el conjunto de la coalición elkarrekin podemos vamos a rechazar los presupuestos

legebiltzarkideok queridos ciudadanos voy a presentar la vocación que les hizo triunfar

se convirtieron en su ere moral los ciudadanos se tragaron su patraña en clave electoral

que resume a la perfección lo que estos meses se ha ido cocinando se ha ido cocinando principalmente entre dos grupos el pnv y euskal herria bildu con los presupuestos

porque a pesar de ser un mal plato ciertamente se ha cocinado a fuego lento

aunque desde luego una vez escuchado al consejero esta mañana creo que el plato

hablemos claro de modo que cualquier persona nos entienda estos son unos presupuestos de trileros unos presupuestos para vender humo

normal de nuestro país unos presupuestos pensados en clave electoral

la clave guipuzcoana en la que dos partidos

juegan una partida de póker para ver quién se lo lleva todo

los juegos con fuego de unos y otros los pagamos la ciudadanía normal

y solo resulta cansina se acuerdan cuando el veintiocho de junio

euskal herria bildu en un pleno insólito se negó a obligar al gobierno a retirar

se acuerdan se acuerdan cómo se les echo encima todo el mundo

decían no haber facilitado tal cosa al gobierno y hoy la realidad deja a las claras lo que había detrás

un acuerdo presupuestario casualidad que está estrechamente vinculado a esa reforma de la rgi

seguirán hoy negando la intencionalidad que tuvo aquella decisión en junio

lo que hoy se presenta o se presentaba

a estos presupuestos viene de mucho más lejos y va mucho más allá o pretendía ir mucho más allá porque lo que hoy se presenta como un pase

tiene poco de presupuestario y encima lo que hay de presupuestario es indigno para una fuerza de izquierdas

del pnv es a lo que el partido socialista nos tiene acostumbrados

a tragar como cuando pactó con la reforma fiscal las grandes empresas el año pasado con el partido popular y es

y parece que tristemente o no también en el futuro parecía que iba a tragar euskal herria bildu y qué es

lo que se ha debatido qué es lo que se ha tratado de cocinar

de políticas no liberales externalización de servicios públicos de mantenimiento de recortes sociales de políticas laborales a la medida de la patronal

y es que lo que hoy se anda trapicheando son los presupuestos que el año pasado se firmaron con el partido popular y los presupuestos de confebask

con números grandilocuentes con titulares tan deslumbrantes como vacíos sobre las pensiones

de los que unos y otros hablan no son precisamente la bomba de lo social

como la versión que han intentado modificar euskal herria bildu estos presupuestos se mantienen

las rebajas fiscales a la patronal las subvenciones a los colegios del opus y se siguen sin revertir los recortes en salud en educación

ante este despropósito pues lo tenemos muy claro

que no estamos desesperados por colocar cargos en gobiernos para subsistir como el partido socialista

que nuestra apuesta es ser alternativa y dar una alternativa a este presupuesto

propuestas que presentábamos hemos escuchado estos meses hablar de ofertas contraofertas rebajas y negociaciones como si estuviéramos en un bazar hoy da igual que sea la versión

saldos en liquidación la izquierda vasca tenemos claro lo que opinamos

del modelo económico y social del pnv no es que no sean las nuestras es que ese modelo y esas políticas son nuestro adversario y ni las apoyamos ni les damos trámite ni una ni dos

once votos en contra once votos de izquierda y los únicos once votos de izquierda que se van a ver hoy en este parlamento

tenemos perfectamente clara cuál es nuestra política de alianzas

es la de ofrecer un acuerdo a las fuerzas progresistas es la de ofrecer una mano tendida para que bildu

y hagan lo que les dicen sus programas y lo que les dicen a la ciudadanía que les vota

queremos construir gobiernos que cambien euskadi y no pactos de país continuistas con un pnv que está al servicio de petronor

y de confebask porque hoy

los trileros del pnv hablan de subir

cincuenta euros a las pensiones más bajas tampoco escucharán a bildu decir que esto está doscientos treinta euros por debajo

que exigen los y las jubiladas de nuestro país tampoco se dirá que esta negociación se basa sobre una propuesta insolidaria que trata de proteger a unos pocos sin darse cuenta que abandona a otros muchos y sobre todo a otras muchas

que acuerdan destinar uno millón de euros contra la brecha salarial o subir un millón de euros contra la brecha salarial lo que no se dice es que al mismo tiempo se mantienen

son perversas para las mujeres porque profundizan precisamente en la brecha salarial sacando a las mujeres del mercado laboral para que vuelvan

a futuro qué pesaran más los treinta millónes que perpetúa la brecha salarial o el millón que algunos dicen negociar para combatirlo

y sonrojante hoy no van a decir nada sobre la naval nada sobre su rescate público

el otro día yo estuve en una manifestación el señor casanova estuvo en una manifestación el señor pastor

pero hoy estos dos grupos autodenominados de izquierda con lo que han dicho hasta este momento no se una vez escuchado el consejero eso cambia han planteado darle pase a un presupuesto

en el que se destinan cero euros para el rescate de la naval

poca coherencia poca coherencia no sé si se les ha olvidado ya que estuvieron en esa manifestación no sé si el señor pastor ese día

de gobierno hoy también hablan y han hablado de empleo el empleo como eslogan

vacío se puede hablar de compromiso con el empleo cuando estos presupuestos no contemplan ni una sola medida de inversión adicional

estamos hablando de dos de las comarcas más castigadas aún por la crisis y por el paro y en los cambalaches que estamos viendo estos días no hay nada para ellas solo olvido y silencio ni los presupuestos de pnv ni los cambalaches de estos días aportan nada al empleo nada al empleo de calidad

en pocos días doscientos cincuenta trabajadores y trabajadoras de la naval irán

en plenas navidades y con ellos y con sus familias

miles de empleos de industria auxiliar vinculado a los astilleros y otros tantos miles de empleos de comercio local de la margen izquierda

saben qué representan estos presupuestos para todas estas familias oficializar el cerrojazo

van a ayudarles y van a poner el cerrojo en la persiana de la margen izquierda y quienes le sigan serán cómplices del sufrimiento y de la precariedad de la margen izquierda

pero todavía hoy alguien tendrá la falta de escrúpulos de subir a esa tribuna y gritar indignado que defiende la naval

o con la retirada de la reforma de la rgi igual que hizo el partido socialista con la ilp contra la segregación escolar qué poco

qué pena me da pensar en lo que podríamos construir juntas y en las oportunidades que estamos dejando pasar en pro de la construcción de un país que deja a su gente atrás qué pena me da de verdad pero más allá

y en el que algunos se quieren embarcar más allá de esa necesidad el partido socialista en su necesidad

su partido bueno la realidad es que hoy euskadi podría haber tenido otros presupuestos unos presupuestos dignos de ser llamados sociales unos presupuestos que no fueran

hoy en vez de uno social y de izquierda parece que algunos se van a plegar precisamente a ese modelo del pnv porque en el cambalache que hemos vivido estos días no hay

es otro modelo alternativo al del pnv ese otro modelo nosotros lo concretamos en quince puntos de sentido común que concretan

y que ofrecían soluciones viables para los problemas que tiene nuestro país

quince medidas que empezaban con el rescate de la naval que ya he mencionado ese que el gobierno del pnv y pse decían que era imposible que luego dijo que solo si aparecía un inversor privado y ahora

el otro día miles de trabajadores y trabajadoras de este país gritaban en unas calles precisamente adornadas con las luces de navidad lehendakari vete tú a cádiz

casi que me va a permitir hacer extensiva esta invitación a la señora mendia

lo siguiente que planteamos era precisamente un macroplan de empleo uno que apostase por aquellas comarcas más dañadas por la crisis como ezkerraldea meatzaldea enkarterri aiaraldea

para estas comarcas las partidas son las de siempre las de siempre

que era llamativa la ausencia de novedades en este ámbito

un plan de empleo que incidiese en sectores económicos con gran capacidad de creación de empleo y empleo de calidad

hablamos de cuidados de las personas dependientes el impulso de la economía social y solidaria

y producción doméstica de energía renovable de esto no hay ni rastro en unos presupuestos que en empleo son planos son grises no hay novedad de lo mismo proponemos un plan de choque contra la escalada de precios de la vivienda y con qué nos encontramos con que hay presupuestadas ayudas solo para mil personas mil personas cuando son decenas de miles de personas con dificultades para acceder al ejercicio de un derecho fundamental

muy sociales proponemos revertir

y qué nos encontramos con que ocho años después estos recortes seguirán vigentes para la gran mayoría de la gente parcelamos la mejora

imprescindible sí pero creen de veras que este es el único camino posible

que hemos salido de la crisis pero parece que no para todos hay dinero para dar pluses para altos cargos

pero no para ayudar a las familias más necesitadas de este país y por si fuera poco hoy se quiere dar pase a una propuesta

que lo que en euskadi necesita una persona para no caer en la pobreza será diferente en función de la edad si usted es una mujer parada de larga duración de más de cuarenta y cinco años usted tendrá que arreglárselas como hasta ahora con poco más bien

este cambalache de estos últimos días no va a ayudar en nada cero euros para las personas paradas mayores de cuarenta y cinco años cero euros para jóvenes que quieren emanciparse y por supuesto

vaya propuestón que se han sacado de la manga por no hablar de lo paradójico que resulta

que quiere potenciar los sistemas privados de pensiones y lo pretenden en nombre de los jubilados y las jubiladas de las calles

la realidad es que para perpetrar este cambalache presupuestario han querido y quieren tomar como rehenes a las personas pensionistas pero me temo me temo

una vez escuchado lo que he escuchado hoy creo que con más certeza puedo decir que les va a salir el tiro por la culata berdintasuna

de petronor y de la patronal y acabo ya

termino con otra es un poco más vieja pero igual de actual

en ella se denuncia cómo a veces en la política

decía que lo que antes ser muy mal permanecer todo igual y hoy resultar excelente pues en esas parece

una parte de la izquierda de este país en tragar con todo aquello que hasta hace dos días criticaba nosotros esperamos que piensen

legitiman seguir adelante con la base del partido popular con el camino trazado por confebask y no por la ciudadanía y desde luego en elkarrekin podemos lo tenemos

las políticas neoliberales y antisociales del partido nacionalista vasco nuestro objetivo son hacer gobiernos de cambio con euskal herria bildu y con el partido socialista y los números dan

uno quitarse el complejo de muletas del pnv y la segunda

lo social y no a relegarlo como llevan un año haciendo en este parlamento sacrificando muchas veces lo social

hoy veremos cómo algunos han puesto al servicio de la construcción de una nación

sí gracias presidenta buenos días consejeras consejeros va a ser verdad señor martínez que está usted en la estratosfera por lo que hemos

de su disertación en la mañana de hoy mire desde el grupo socialista vamos a ejercer la responsabilidad que nos corresponde y la que hemos ejercido siempre en euskadi

que es para lo que en realidad nos esperan a las fuerzas de izquierdas los socialistas con estos presupuestos proponemos un plan de emancipación para los jóvenes vascos que no se ha puesto en práctica en ningún otro sitio con esta ambición proponemos poner en marcha un plan de lucha integral contra la brecha salarial que ha sido demandado

de forma unánime proponemos más garantías a todas y cada una de las mujeres de este país que se sienten amenazadas por el hecho de ser mujeres y además nos exigen no dilatar las respuestas que reclaman proponemos mejorar la situación de muchas personas a las que no hemos conseguido rescatar de su dependencia

y proponemos cumplir el compromiso pactado con los empleados públicos

su nivel adquisitivo y quienes quieran hacer realidad y efectivas estas propuestas no deben plantear hoy la devolución de los presupuestos para dos mil diecinueve como hace elkarrekin podemos podrán proponer mejoras pero no bloquear aquello que sí va a influir en realidad en la vida de las personas y eso es lo que hemos hecho

una red de protección social única en españa

un espacio que propicia en definitiva el progreso y la cohesión social para que vayan de la mano

en este proyecto alternativo es un dos por ciento del total del presupuesto no parece muy creíble como proyecto y de cambio ustedes no plantean con su enmienda a la totalidad un modelo económico y social vasco alternativo al que existe en euskadi y que está pactado entre nacionalistas y socialistas para esta legislatura recordar que este gobierno está en minoría y recordar a los partidos que lo apoyamos no aporta nada más que la visión pacata

que por tercera vez huye de la mesa de negociación presupuestaria y los socialistas vascos volvemos a tener la impresión de que la enmienda de elkarrekin podemos más que destinada al debate presupuestario está orientada a llenar algún titular que otro o a mover algunas consignas en las redes sociales

coincidiendo en su momento con el día en que se publicaba en los medios de comunicación

que no contribuían lo estaban haciendo desde este año pues en fin

cuestionar la política de endeudamiento y equilibrio financiero cuando se acaban de aceptar criterios similares para el conjunto de españa pues tampoco parece muy coherente y si entramos en las cuestiones

lo que citan son asuntos que ya han sido acordados en este parlamento que los han pactado incluso con el gobierno y a los que ahora sin más les hacen

del gobierno vasco que están en el presupuesto para dos mil diecinueve si hay en euskadi un plan de choque para las comarcas desfavorecidas es porque otros antes nos ocupamos de impulsar un acuerdo que luego ustedes suscribieron

en los presupuestos para dos mil diecinueve si hay una intervención pública en la naval será en los términos acordados unánimemente en este parlamento

si aquí hay un derecho a la vivienda en euskadi es porque otros hicimos las tareas con anterioridad antes que ustedes entraran en esta cámara y además nos encargamos de desarrollarla

como un derecho subjetivo con su programa también para desarrollarlo en los presupuestos de dos mil diecinueve y no se puede sostener con un mínimo de rigor que en euskadi no hay rastro del derecho a la vivienda porque dónde lo hay en realidad en barcelona

en navarra no verdad no se puede frivolizar el debate

de falta de compromiso en la lucha contra la precariedad laboral y en la importancia de la inspección de trabajo cuando este año se han redoblado los esfuerzos y solo en el primer semestre

habían conseguido transformar sus contratos en indefinidos planteándose también en los presupuestos de dos mil diecinueve un incremento en la dotación de recursos humanos y económicos para seguir impulsando este objetivo no se puede decir

que no se recortan los sueldos de los altos cargos quienes no han pedido nunca que se les recorten sus ingresos como parlamentarios o parlamentarias

y el populismo se pueden enfrentar salarios a ayudas y prestaciones económicas no se puede hablar de perversidad en políticas de igualdad cuando desde elkarrekin podemos se han avalado las medidas previstas

que tuvo lugar en esta cámara sobre la política familiar y el desafío demográfico medidas que entre todos supimos armar ampliando

y no se puede frivolizar la acción del gobierno sobre las políticas hacia las mujeres que sufren violencia de género se pueden y se deben mejorar los recursos cómo no pero no decir que estos no se incrementan en partidas concretas cuando lo hacen un cuarenta por ciento no se puede justificar una enmienda a la totalidad

que no tienen contestación y cuando el setenta y siete coma nueve por ciento del presupuesto se dedica a políticas sociales se las ventilan ustedes con un llamado se inflan partidas el gobierno infla presupuestos y los únicos que tienen la patente del rigor

y yo me pregunto no es inflar el presupuesto sumar como hacen ustedes quince millónes para la naval sin contar previamente con un plan de viabilidad

pretender como hacen ustedes que se incluyan treinta millónes para zonas desfavorecidas cuando ya hay un plan de choque en marcha y otras iniciativas integrales en una actuación del gobierno que es interdepartamental y además trasversal eso no es inflar

por muchas lecturas de su enmienda que hemos hecho es dónde está su modelo económico alternativo de cambio cualitativo del modelo productivo y mejora del empleo y lo leo porque así lo ponen ustedes en su enmienda a la totalidad

al plan marco por el empleo y la reactivación económica que presentó el gobierno hace más de un año y medio están planteando ustedes apuesta por los servicios

no es verdad ustedes saben que no es verdad que eso no está haciendo el gobierno

internacionalización emprendimiento que hemos aprobado en esta cámara

qué son para ustedes ciencia ficción justifican sus planteamientos sobre bases equivocadas porque euskadi es líder en materia de cooperación porque nunca hasta ahora la plantilla de inspección laboral había estado más dotada de medios personales y económicos

las ayudas de emergencia social porque se atiende la cuestión de la pobreza energética que por cierto los socialistas impulsamos en su momento y logramos desde la oposición introducir

para las personas sin hogar en infraestructuras se sigue apostando de forma decidida por el transporte sostenible

ferroviarias y no ferroviarias porque en salud cuyo presupuesto representa el treinta y dos coma dos por ciento del total del presupuesto para dos mil diecinueve en euskadi

se defiende la universalidad del derecho a la salud se pretenden consolidar las redes locales de salud impulsar programas de empoderamiento de pacientes y fomentar medidas

al copago farmacéutico el sistema sanitario público está centrado en el ámbito asistencial

humanos y económicos la gestión externa esa de la que hablan ustedes en su enmienda es para áreas complementarias

lo que no pone en riesgo ni en cuestión el sistema sanitario público vasco la financiación de e i te be se hace a través del contrato programa siguiendo normativa europea y española se mantienen también en estos presupuestos los compromisos del gobierno vasco en torno al euskara y el objetivo de promocionar el emprendizaje de las personas adultas culminando la gratuidad del mismo

en materia de cultura también se plantean siete líneas de trabajo activas todas ellas de carácter estructurante y dirigido al sector y miren dos últimas reflexiones una lo perverso para la igualdad no es desarrollar

y todas acordamos en este parlamento que debía hacerse en multitud de programas miren lo perverso para la igualdad es despreciar un esfuerzo que estamos haciendo de forma conjunta porque alguien se quiera arrogar la representación en esta cámara y segunda y última reflexión los presupuestos no son perfectos sin duda

los presupuestos pueden mejorarse y se ha intentado negociar con elkarrekin podemos antes de presentarlos pero elkarrekin podemos no ha tenido ninguna intención de negociar nada

han desechado las propuestas de mejora que el gobierno les ofrecía en empleo en protección social en igualdad en juventud esas áreas muy propias de la izquierda no de su izquierda de la izquierda

áreas que son importantes y fundamentales para la calidad de vida de la sociedad vasca y ustedes han decidido que no entraban en esta negociación que daban un portazo que salían por tercera vez huyendo de la negociación que era mejor acudir a titulares y

en que son la izquierda vasca la única izquierda vasca y dejar a los sectores más vulnerables lejos de lo que puedan ser unas mínimas soluciones de sus problemas hasta ahí esa ha sido su aportación real

de la sociedad vasca de los colectivos que configuran la sociedad vasca por tanto menos teatro más política más baño de realidad y dejen ustedes otra vez de volver a viejos dichos

miren no ofende quien quiere sino quien puede y pocas lecciones pocas por no decir ninguna

ustedes a los socialistas vascos de qué es ser de izquierda de qué es

de qué es dar soluciones a los problemas de la sociedad vasca desde la izquierda a los socialistas vascos ustedes ni una sola lección

horrible todo es apocalíptico esto baina zer sinesgarritasun deuko zuen diskurtso horrek

es la patología de la derecha ir continuamente de forma dogmática hacia atrás y el infantilismo es la patología de la izquierda

es confundir continuamente la ilusión con la realidad

ejercicio de ilusionismo político un auténtico ejercicio de infantilismo político

el consejero arriola decía yo voy por españa y soy un consejero envidiado verdad que lo decía usted señor arriola

que es que me envidian el resto de consejeros del resto de comunidades autónomas y decía arriola oiga señores de podemos

entre ustedes y nosotros en madrid no nos llega

con un discurso apocalíptico con un discurso apocalíptico ah ze desastrea

se le ha quedado frio el discurso zelan erantzun zuri

beitu zer esaten izan duzun las políticas sociales son nuestro adversario no es que no estemos son

pablo iglesias ha estado con usted y con el lehendakari en una reunión la consejera del ramo

se ha reunido con la consejera de euskadi para aprender de las políticas que están haciendo aquí se lo décimos una y mil veces

decía es indigno desde el punto de vista presupuestario pero qué es indigno que nos gastemos tres mil ochocientos millónes

es indigno que nos gastemos dos mil ochocientos cuarenta y cinco millónes

en políticas educativas es indigno que nos gastemos más de mil millónes en políticas sociales

más del setenta por ciento a políticas de salud a políticas sanitarias a políticas educativas o sea es indigno seguimos no son la bomba en lo social pues no sé la bomba en lo social porque le estoy dando datos son ustedes manipuladores natos de la información cogen una palabra

contra nosotros lo han hecho con el tema de las políticas perversas manipulando por completo la intención del informe de género

porque lo que dice efectivamente como ya se ha dicho aquí es que esas políticas que se incluyen con un incremento de diez millónes de euros para favorecer

las familias lo que tendremos que hacer es reflexionar porque al final quienes más se acogen a esas medidas son las mujeres y por tanto tendremos que de alguna forma reflexionar qué tenemos que hacer para que los hombres

de eso a decir que las políticas de igualdad que se están planteando son perversas eso no tiene otro nombre es manipulación pura y dura dicen

hay en euskadi cuántos hay

del esfuerzo educativo va dirigido al sistema público

eso es una manipulación hombre y luego ya solo por peso como partidas que ha criticado

aipatzekoa lo que destinan a subir a altos cargos

digital ciento noventa mil los altos cargos que es la antigüedad

la antigüedad qué injusticia que unos cobran y otros no como nosotros nosotros y nosotras
pues lo que sería el compensar no todos claro no mesedez

mesedez y los que somos funcionarios sí precisamente la intención de esto es quitar ese agravio

oye el total de partidas tremendamente injustas

hay que tener solo esto lo que el consejero ha presentado aquí solo esto

depende de ellos que podamos sacarlo adelante depende de ustedes que podamos sacarlo adelante y depende de ustedes que podamos sacarlo adelante

pero vamos dicen hay para todo esto pero no hay para familias claro compensamos qué quiere que repartamos doscientos cincuenta mil así eso es lo que va a sacar cuando estamos hablando de un presupuesto de casi doce mil millónes de euros hau da garrantzitsua eta aukera dagoela

zuek aipatzen duzue nosotros queremos presupuestos sociales laborales y feministas pues tienen aquí si quiere le voy diciendo

lo tendrán rgi considerarán

a las pensionistas a las personas pensionistas que más dificultades económicas tienen será una partida social verdad digo yo pero vamos a ver las que son también laborales y feministas lehen aukera jóvenes es laboral

inserción laboral dirigido a colectivos con dificultades retorno juvenil gazteak ámbito laboral

por cierto señor martínez que usted se refería y están continuamente con el plan comarcal de las zonas desfavorecidas bien

por completo se les olvidó en madrid y a última hora eso castelo se lo ha comentado más de una vez a última hora

y voy a ver si meto porque ustedes cero patatero no se acordaron de nada política fiscal están diciendo pues bueno bastante más humilde

zonas desfavorecidas están incluidas en el presupuesto partidas que tiene que haber y hay un plan que lo conocemos perfectamente porque la consejera lo presentó aquí y como les comentó

tiene que ver con la dotación presupuestaria que aquí se pueda hacer sino con los proyectos de viabilidad que en su caso pudieran surgir y que eso se pudiera lanzar adelante

señor martínez el departamento les ofreció a ustedes la oportunidad de poder incrementar las partidas que se destinaban a eso y a ustedes les parecen

de tener discurso por favorecer eso porque ustedes hacen la política

y a eso están dedicando su esfuerzo simplifican de tal manera todo lo que están haciendo para que entre en un tuit ciento cuarenta caracteres y es que no se puede hacer política con ciento cuarenta caracteres

se puede hacer política rigurosa responsable con ciento cuarenta caracteres en la política el equilibrio es una gran virtud

le voy a decir que tenemos que hacer políticas equilibradas racionales buscar el punto de encuentro de todo lo que nosotros y nosotras

responde al programa de gobierno del partido nacionalista vasco y del partido socialista porque para tener otro programa de gobierno lo que hay es ganar las elecciones o ser capaces de llegar a un acuerdo de gobierno

decidir si potencian determinadas políticas o no las potencian y esas políticas serán el punto de equilibrio la intersección del programa de gobierno con sus propuestas eta hori da

qué han hecho ustedes en madrid para mejorar las condiciones de vida de las personas más de lo que haya en euskadi qué es lo que han hecho

nos habéis dicho también tanto corcuera como usted como el consejero

en estratosfera a cielo abierto ez dakit

y a catorce que no por motivos políticos no económicos ni porque no encajaran en el presupuesto porque nos tratáis de explicar las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa y

como planteando que no entran en el barco presupuestario

por lo menos tengan el valor de venir aquí y admitir que el problema que tienen es político que no les gusta lo que nosotros planteamos que no les parece

que descompensa ese modelo equilibrado de ustedes hacia los más ricos

que su política equilibrada equilibrada para unos se la desequilibran las propuestas de elkarrekin podemos

con nuestras enmiendas digan lo que digan nosotros presentamos una alternativa al presupuesto y además jugando dentro de un muy injusto marco de ingresos que es el suyo

la plataforma que propusimos eran quince propuestas concretas realistas una alternativa centrada

entenderán que no vamos a validar unos presupuestos que estaban diseñados para acordar con el pp y no con la izquierda desde luego y que no vamos a poner parches a situaciones estructurales que es lo que nos ofrecían cuando nos sentamos en la mesa

parches muy pequeñitos a situaciones estructurales

las personas pensionistas son las que más saben de pensiones y ellas necesitan alternativas reales

que no se concretan y que solo reproducen soluciones parciales disolviendo la atención sobre el foco importante que es el sistema público de pensiones

que arreglen el derecho y el sistema justo y no se pongan parches a través de una prestación social

y que se propone abandonando a una gran parte de la población que es la que peor lo pasa y sacando además un gran titular de fondo vacío

que los nuestros hablamos de jóvenes tampoco merecen estos presupuestos los jóvenes gure gazteak eta ezta gure emakumeak

si no se aprueban estos presupuestos algo que en nuestras quince medidas estaba la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios bastante por encima de la propuesta que hacen ustedes

pero una propuesta que ni siquiera se plantearon contemplar ni siquiera se plantearon contemplar si hablamos de educación o de otro tipo de partidas no se trata de hablar de la cuantía o de cuantos colegios del opus hay o de cuantos menos se trata del modelo

que prioriza la educación pública y la escuela pública

pública y concertada y que además es segregador con nuestra enmienda a la totalidad y en parte con nuestras enmiendas parciales

planteáis una euskadi que se basa en las aspiraciones de confebask y nosotros lo que proponemos es una euskadi social y una euskadi solidaria

y lo que necesita la juventud para que puedan volver y para no tener que irse la que necesitan las personas trabajadoras

de empleo de seis meses sin continuidad y sin opciones de estabilidad y de futuro y queremos y contraponemos un modelo de euskadi que cuente

estos presupuestos digan lo que digan es el modelo de siempre el que desarrolla una sociedad a dos velocidades

se merece un aplauso porque le ha tocado otra vez le ha vuelto a tocar la manzana podrida al tener que defender el proyecto

en los grandes titulares que ha querido vender se le ha olvidado mencionar otros elementos

señora gorospe también se le han olvidado que los servicios públicos no van a

que educación y salud no pueden seguir con presupuestos como los de hace diez años

la consejería de arriola o de darpón a otros consejeros en el estado

a mucha distancia de la media europea en investigación y desarrollo

yo creo que sinceramente deberán pararse a pensar un poco a dónde quieren llevar este país porque si nuestro camino es el infantilista el suyo es el reaccionario

tratar de articular gobiernos de cambio entre las fuerzas progresistas y por último pues voy a repetir lo último que he dicho antes nuestra mano la mano de la izquierda vasca para otro modelo para un giro social está tendida

gracias presidenta lamentablemente señor martínez oferta de mano tendida no es creíble no es creíble por lo que cuenta y por lo que deja de contar por lo que hace y por lo que deja de hacer con estos presupuestos dos mil diecinueve mire ustedes han presentado una enmienda para la evolución de los presupuestos no han presentado unos presupuestos alternativos

o presupuestos alternativos no lo digo porque es bueno poner los conceptos y ustedes no han hecho un presupuesto alternativo han presentado modificaciones al presupuesto no han hecho un presupuesto alternativo no haga gestos porque es que es así

mire cuando alguien quiere cambiar algo y le hacen una oferta del gobierno vasco pública y dejan ustedes se van de la mesa ante esa oferta que les hacen y dejan materias de

con planes de actuaciones dirigidos a la revitalización de comarcas desfavorecidas con actuaciones integrales destinadas a mejorar el empleo y la actividad con una dotación de cuarenta millónes de euros cuando dejan por el portazo que le dan a la negociación la protección social de lado un incremento del tres coma cinco por ciento para la renta de garantía de ingresos en dos mil diecinueve y otro

cuando dejan el tema de la igualdad cuando dejan el tema de la juventud cuando estas ofertas se van ustedes de la mesa de negociación caen y entonces ustedes

a hacer su discurso porque uno tiene que aguantar si quiere conseguir cosas pero aguantar una negociación

es que euskadi avance en esos colectivos que son más vulnerables y con su enmienda de devolución que no de presupuestos alternativos ustedes ya lo ha dicho el consejero azpiazu pero van a permitir o permitirían

puesto en marcha todavía los bloques quirúrgicos de bidasoa y de zumárraga

afectará a la concertación con agencias de desarrollo local a la contratación de jóvenes a través de las entidades locales en desarrollo económico el plan de choque de zonas desfavorecidas no podrá ser llevado a cabo con el incremento presupuestario que se plantea en educación no podrán ser puestos en marcha los incrementos en materia de personal en base a los convenios que se han llevado a cabo ni tampoco el tema de las haurreskolak

en comercio los programas que se habían consensuado con todos los agentes del comercio y que resultaban estratégicos para ello tampoco podrán verse en marcha porque no se llevarán a cabo los incremento olvídense también del plan de choque para reducir la brecha salarial eso que tanto nos ocupa y nos preocupa lo dejamos de lado con la devolución de los presupuestos en justicia nada de nada del incremento de profesionales del servicio vasco de gestión de penas

de violencia contra la mujer en fin una serie de cosas que no se podrán llevar a cabo si estos presupuestos se devuelven y yo sigo diciendo lo perverso

y donde se comparten incluso hasta soluciones a proponer hablaba antes elkarrekin podemos de una fiscalidad regresiva que se estaba llevando a cabo por este gobierno

es ahora que haya un plan evaluable contra el fraude que paguen más las sociedades que paguen más quienes más tienen pues viva la innovación política plena

el año dos mil diecinueve y esperamos que podemos ponga encima de la mesa actuaciones concretas que puedan hacernos avanzar hablaban ustedes de que son la izquierda

las cuentas y la oficializaron en el pleno de política general en el mes de septiembre

de que podemos es ahora la izquierda vasca después de haber dado por acabada aquella fase

del ámbito político para realmente configurar de qué iba elkarrekin podemos hasta que el gabinete estratégico decidió que a partir de ahora eran la izquierda

pura e inmaculada porque ustedes no se mojan para nada no vaya a ser que les salpique algo que nos les permita estar libre de mácula

debiera hacer como referente que siempre ha sido de transformación de la sociedad para mejorar la vida y no lo hacen por postureo no lo hacen porque cuando vieron la posibilidad de un sí y de sentarse a negociar y de avanzar en la negociación ustedes cogieron

se fueron y cerraron la puerta y creo que elkarrekin podemos ha vuelto a confundir el trámite de hoy porque no estamos en campaña electoral señor martínez eso ya paso

escaños y decidir qué hacer con ellos los socialistas ser útiles para la ciudadanía por lo tanto estamos en gobierno para seguir siendo útiles a la ciudadanía yo sigo diciendo que ustedes representan esa izquierda intransigente y patata que prioriza sus intereses partidistas

impidiendo a euskadi avanzar en progreso en igualdad y en justicia social

anteriores unos diez millónes más debido principalmente a que se han incluido esas medidas de conciliación en el departamento de empleo y políticas sociales

no obstante hay que subrayar la conveniencia de reflexionar sobre el impacto real que estas medidas tienen sobre la vida de las mujeres y neutralizar

acogen a estas medidas el efecto perverso que podrían crear hori da esaten duena las políticas sociales que no se ven para nada

sin ventanas y son los mismos sitios a los que ahora ellos han venido

que lo que pasa es que se trabaja con discreción que es lo que se tiene que hacer en este y en todos los ámbitos profesionales de todos los sitios que durante todo el proceso de negociación

ha podido comentar se ha trabajado con discreción no en sitios oscuros y con absoluta transparencia ahora hoy ha venido el consejero a presentar

de al sitio al que han llegado cuál ha sido ese proceso negociador que se ha llevado durante todo este tiempo argitasunez diskrezioz

esfortzua egiten duena da el ganar está sobrevalorado lo importante es esforzarse eskerrik asko eskerrik asko gorospe

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno

ubicarnos en qué escenario estábamos y yo creo que tiene razón

estamos en mitad de la legislatura nosotros acordamos y apoyamos

para el año diecisiete y para el año dieciocho este que está vigente que eran presupuestos que dieron estabilidad crecimiento empleo

y nosotros creemos que al país y a los vascos les ha ido bien ahora este escenario que tenemos que nos decía hoy el señor consejero

porque es el escenario que el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco ha buscado no lo hemos buscado otros es el que ustedes han buscado yo le voy a dar

uno apoyaron la desestabilización del gobierno de españa para poner un gobierno títere que manda cartas unas a bruselas

decidieron que había que votar en la ponencia de autogobierno las bases que habían acordado con bilbu para la independencia cosa que se habían negado hasta ese momento en esa ponencia de autogobierno pero ya en julio sí que había que votarlas

tres recibimos la ejecución de los presupuestos después del verano del año dos mil diecisiete cuatro nos sacan el programa herenegun que blanquea a eta y a su entorno que evidentemente es el socio

cinco empiezan a negociar los presupuestos con bildu antes de que el propio gobierno apruebe sus presupuestos seis participan

en san sebastián con todo el partido nacionalista vasco en pleno en esa pantomima

en el pleno las bases independentistas aprobadas con bildu señor consejero no me diga el pnv no no todos los que estamos aquí incluido el gobierno

califican a la constitución española de ilegítima y antidemocrática

es decir esta comunidad autónoma existe y este gobierno existe gracias a esa constitución que ustedes

hace escasamente una semana y nos encontramos en este escenario hoy en el día de hoy y yo señor consejero en fin

por lo visto siguen negociando los presupuestos y

queremos querer seguir creyendo en el sistema no y que el sistema funciona

y que no estamos asistiendo aquí a un teatrillo por parte del gobierno y por parte de bildu cuando dos quieren negociar negocian y acuerdan

aquí volviéndonos locos durante no sé cuánto tiempo

va la propuesta que el propio señor consejero ha hecho hoy aquí qué partidas va a disminuir usted en el presupuesto si llega a ese acuerdo

y encima de carácter anual por qué porque es la que fija los criterios y las políticas que va a desarrollar el gobierno

y nos decía el señor consejero que este presupuesto de este año tiene más enjundia económica pese a que ya notaba una desaceleración tiene más enjundia económica que los anteriores y tengo que decirle que sí

a lo que habíamos acordado para el diecisiete y para el dieciocho sí señor consejero en dirección contraria y probablemente sea producto de los incumplimientos de estos acuerdos que hicimos para el diecisiete y que hicimos para el dieciocho

nos dice la representante del pnv que aprobar los presupuestos depende de nosotros de podemos de bildu

del gobierno depende algo que se aprueben o no unos presupuestos de entrada tendrá que ser un gobierno creíble

si no los cumple que explique por qué pero que no nos diga que los ha cumplido y segundo depende de la propuesta que haga pues claramente se ve si busca

u otros porque evidentemente nuestro modelo de sociedad y político no tiene nada que ver ni con el de podemos ni con el de bildu

porque todos los comunistas tienen más o menos el mismo hasta donde yo sé y evidentemente es radicalmente distinto y por qué es distinto pues porque nosotros en los acuerdos que hicimos

que se incumplió y la ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral que se incumplió

por cierto siguen ustedes manteniendo en el presupuesto incumpliendo el acuerdo que hicimos el recorte del cinco por ciento a esas ayudas pero fíjense

qué grado de cumplimiento tienen que incluso una de las pocas enmiendas que bildu ha presentado diciendo dónde hay que reducir gasto y dice que hay que reducir gasto de diecisiete millónes de euros

y tienen razón porque es que no las van a ejecutar porque no van a ejecutar

y eso es lo que están negociando ustedes y cuando aquí a todo el mundo se le llena la boca diciendo que hay que la igualdad de las mujeres y de los hombres la igualdad de salarios hombre la mayor medida

es las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral pero claro cuando hoy mismo esta mañana hemos oído

que prácticamente las cobren el noventa y nueve por ciento las mujeres entonces hay que incentivar

así que vamos a bajarlas o no ejecutarlas

perjudicando a las mujeres no veo yo sus

de igualdad en ningún sitio sino que vemos todo lo contrario en educación que tanto nos han citado en el anterior debate pues evidentemente nosotros sí pedíamos y pusimos enmiendas para reforzar las escuelas infantiles de cero a tres años

no están o que la mitad de las familias de los que pagan impuestos

verdad cincuenta por ciento de los alumnos están en centros concertados que reciben un tercio

aquí en este presupuesto especialmente el de este año se perjudica a las clases medias que trabajan y pagan impuestos y financian todo esto también en educación que por cierto

idioma extranjero es fundamental en la educación pero bueno

para qué vamos hablar de las inversiones el presupuesto más inversor según el consejero de los últimos años pero claro con la crisis había que reducir de las inversiones

no solo acordada por unanimidad en este parlamento hace seis meses pactada con nosotros en los presupuestos durante dos años para que ahora venga el gobierno y nos diga que no se va hacer que no se van hacer esta es su credibilidad

como las ayudas a las familias y es evidente que el acuerdo con bildu para liquidar el estatuto y la constitución española afecta a todo

nos afecta económicamente y que ustedes han buscado que es lícito pactar con bildu lo cual oiga

pero no nos tengan mareándonos aquí durante dos meses o les da vergüenza

qué problema tienen en pactar unos presupuestos señor consejero

el presupuesto que usted nos trae que se incrementa en más de trescientos millónes

aunque eran más de seiscientos respecto al presupuesto inicial pero trescientos millónes se lo dejo en trescientos millónes sin embargo su previsión de liquidación de este año

dice que le van a sobrar casi trescientos porque usted ahorra mucho ahorra mucho en las partidas que evidentemente habían pactado con nosotros por lo tanto ha presentado un presupuesto para el año que viene

en quinientos treinta millónes de euros sus datos sus cuentas

y en inversiones usted nos dice este gobierno va a invertir más que el año pasado sí del dinero propio pero como se le rebaja la partida de la y como se le rebaja

resulta que este presupuesto tiene quince millónes de euros menos no de los ejecutados de los previstos en este presupuesto

millónes de euros más y dieciocho menos en inversión

ese dinero los quinientos treinta millónes de euros a gasto corriente a financiar el gasto corriente del gobierno vasco íntegramente ni un euro a inversiones y empiece usted hablando claro nos decía hombre es que yo creo que es una broma nos decía qué puede pasar si no se aprueban estos presupuestos y nos dice

con la prorroga le vale las inversiones en los hospitales si no han ejecutado ninguna de las que pactaron con nosotros les vale la prorroga les vale

la prorroga a estos presupuestos nos dice el señor consejero de hacienda no y los sueldos de los funcionarios

y que no la van aprobar y van a mantener al gobierno títere sin presupuestos y como sea

que solo puede subir el uno coma cinco oiga pues ya está previsto en la prórroga de estos presupuestos

están recogidas en los presupuestos de este año se prorroga sin ningún problema pero vamos

quince quince

un poco de seriedad a eso sí las pseudoembajadas y tal que el otro día vinieron por aquí incrementamos el gasto en e i te be incrementamos el gasto

y eso los vascos normales digamos que no vivimos de eso de qué nos sirve qué nos aporta nada

absolutamente nada y quiero recordarles que nosotros acordamos también con ustedes que el año que viene que empieza el mes que viene tocaba hacer la reforma del irpf

tengo que volver al hilo de una de las cositas que usted nos ha dicho al principio no estamos en recesión pero el crecimiento está bajando

y está bajando y ahí se ha quedado y eso que significa que esté bajando el crecimiento que vamos a recaudar más o que vamos a recaudar menos

crecer al tres o al dos qué significa que vamos a recaudar más o que vamos a recaudar menos el año que viene pues parece que

datos que usted nos da igual no recaudamos tanto como este año verdad

nos incrementa el gasto corriente y lo consolida en quinientos treinta millónes de euros quinientos treinta millónes de euros para el año diecinueve

bueno ya hemos oído cómo se echaban los tejos con podemos para la reforma del irpf del año que viene

porque lo que también tiene su cosa es que todos ustedes

por eso supongo que los aprobaron todos por unanimidad en el congreso de los diputados que llevaba una reforma del irpf y qué pasa

y la ley de aportaciones señor consejero no lleva usted dos años con superávit

del que le corresponde mientras diputaciones y ayuntamientos no tienen superávit si no necesidades

está bajando el crecimiento pues eso ocurre también pactamos en el año diecisiete

la reordenación del sector público empresarial qué se ha hecho

nada seguimos incrementando el gasto corriente también en todos los organismos

entes que pululan alrededor del gobierno en gasto corriente por supuesto y nosotros

aprueben nuestras enmiendas aprueben nuestras enmiendas claro

son muy simples aprueben nuestras enmiendas y habrá presupuestos

no hay que entrar no nosotros en las enmiendas y en la alternativa

podrían estar de acuerdo verdad en incrementar la inversión en más de cincuenta millónes de euros en aumentar las ayudas a los emprendedores en más de dos millónes de euros en los programas de empleo juvenil que no funcionan en más de un uno coma cinco millón de euros

de apoyo a parados de larga duración en dos millónes de euros o de empleo a las mujeres en otros dos millónes de euros

no están de acuerdo en suprimir el recorte de cinco por ciento a las ayudas a las familias y a la conciliación que siguen planteando en estos presupuestos no decía el lehendakari que la familia era la prioridad de esta legislatura

o las inversiones hospitalarias que tanto le preocupaban al señor consejero centros de salud de aiete de irala

están ya en estos presupuestos pero al señor darpón

como el año pasado claro apruébenlas

si es que lo aprueban alguna vez por qué los centros educativos desde los dos años los privados no son gratis como los públicos

aprueben nuestras enmiendas qué problema tienen o apostar de verdad por la formación profesional dual

por cierto o el inglés o la inversión

o la economía social con otros cuatro millónes de euros y por supuesto oigan por qué los barrios de rekalde y de irala no pueden tener una línea de metro

que se preveía hacer hace veinticinco años veinticinco años que lo aprobaron aquí hace seis meses ustedes y ustedes todos por unanimidad

rectifiquen miren nosotros defendemos evidentemente

y no tenemos ningún problema en decir que sí que nosotros apostamos por la educación concertada que es la que eligen los padres y que pagan sus impuestos

ellos la educación gratuita o qué pasa aquí o qué modelo tiene este gobierno y el partido nacionalista vasco en educación

cuál es su modelo ahora tienen un modelo curioso porque durante dos años el planteamiento de este gobierno

era que la rgi había que quitarla

y aquí señor consejero de la noche a la mañana estamos dispuestos a subir la rgi hasta el catorce por ciento

que afectará a los pensionistas que afecte pero afecta a todos los que tampoco son pensionistas y nosotros no estamos de acuerdo

y financian eso y la gente que trabaja en la calle no en la administración en la calle tampoco les van a subir el dos coma veinticinco ni el quince por ciento y financian eso

eso es lo que tocaba hacer ahora y ustedes están planteando lo contrario pero supongo

o refleja la hondura de las convicciones del partido nacionalista vasco a todos los niveles social económico y político les da igual una cosa que otra les da igual

sin decirnos de dónde van a quitar pero nos lo tememos de donde siempre de la inversión

y de la conciliación porque ya nos conocemos la historia la hemos vivido la hemos visto reflejada en la liquidación

la hemos visto en la ejecución del dieciocho o las honduras del pnv son superiores o tienen un bien superior que como es la independencia todo vale

arre que so qué modelo de sociedad quieren ustedes

a parte del de vascos de primera y vascos de segunda defienden alguno ustedes se creen que nosotros el partido popular se va a prestar a esto de verdad el señor consejero piensa que nosotros en fin el señor azpiazu y yo nos llevamos bastante bien pero de verdad

que nosotros podemos comulgar con ruedas de molino que vamos a hacerle el juego

como piensan ustedes que es compatible que pactemos

no es lo mismo para nada miren en definitiva

porque el presupuesto inicial que han traído es mucho peor que el del dieciocho

susceptible de empeorar muchísimo más con lo que están negociando

y señor consejero todas sus preocupaciones están resueltas con la prórroga de este presupuesto incluido el sueldo de los funcionarios que evidentemente no se pueden subir por decreto

tal y como le dicen sus propios informes que acompaña al presupuesto que nos ha remitido

si y siy si hay presupuestos del estado que digan que hasta ahí

pues parece que no va a haber presupuesto lo cual también es una buena noticia para los vascos y para el resto de los españoles

que por cierto aprobaron ustedes con solemnidad todos por unanimidad

por qué hay que modificar unos presupuestos tan buenos que se aprobaron por unanimidad en el congreso de los diputados nadie va a mejorar eso

y son tan buenos y llevan inversiones aparejadas para el país vasco que casi es mejor también

los presupuestos propios que tenemos en el dieciocho para el diecinueve porque le viene mucho mejor a los vascos

segundo podría invertir el doble de lo que se plantea invertir cumpliendo todas las reglas de gasto

no estaría haciendo guiños electoralistas diciéndoles a los funcionarios que les voy a subir el dos coma veinticinco aunque solo pueda subirles el uno coma cinco

porque aquí hacer rehenes a los pensionistas juegan los dos esos señores y ustedes pero les están engañando a todos porque no es un tema de pensiones

es un tema de renta de garantía de ingresos es un tema de rgi

y nosotros no estamos de acuerdo y eso no es fomentar el empleo sino todo lo contrario

para qué va a trabajar la gente si se puede quedar en casa tranquilamente

porque hasta el año pasado no era el suyo pero este año parece que sí es el del pnv que se va acercando cada vez más al modelo de sociedad de bildu

mire nosotros hemos planteado la enmienda de devolución creemos sinceramente que lo mejor que le puede pasar a este país es que rompan los acuerdos y los pactos que tienen con la izquierda abertzale por mucho que la quieran blanquear por mucho que algunos se empeñen en decir

cuando siguen legitimando el terrorismo habrá que saber también qué entiende el partido nacionalista vasco por sistema y por partido dentro del sistema

a chavales en la universidad este es el socio que ustedes han elegido nosotros creemos que para los vascos

políticamente socialmente y económicamente es un muy mal pacto lo que ustedes están negociando no van a resolver ningún problema

ni de la igualdad de las mujeres sino todo lo contrario nosotros entendemos que lo que sobran son apuestas soberanistas y si de verdad les importan los vascos

si quieren estabilidad política económica y social

respeto al estatuto respeto a la constitución y a las normas que nos hemos dado eskerrik asko damborenea jauna kontrako aurkako txandan sartuko gara

sí gracias presidenta yo le tengo que mostrar señor damborenea un poco mi decepción

hombre decir que la enmienda de evolución obedece a ocho motivos solamente han encontrado ocho se ha esforzado usted muy poquito

es de que no se han consolidado sus aportaciones que los considera usted incumplimientos desde el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y que hay algo que

es que ustedes absteniéndose en los presupuestos los dos años anteriores lo que siempre usted decía es que estos no eran

ni los del dos mil dieciocho y nos conmina usted a que le aprobemos las enmiendas parciales

no se ha dado la posibilidad de la negociación por lo tanto

que si tanto desconfía los incumplimientos de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho

incumpliendo sus enmiendas las aprobadas digo

porque aunque el trámite de hoy es un trámite presupuestario la enmienda a la totalidad del partido popular

de dos mil diecinueve tienen que ver realmente y lo ha dicho usted

tiene que ver con historias de saldar cuentas por otros asuntos de acuerdos y de traiciones según el partido popular

partidos políticos que ocurrieron en los meses de mayo y junio de este año dos mil dieciocho deudas particulares que suenan más

montescos y capuletos que a la realidad política de plantear unos mayores recursos para los colectivos que cada uno consideramos prioritarios en lo que es el ejercicio de la política que tiene que ver más con el tema de un ejercicio de la política

salarial de los empleados públicos con las mayores inversiones sociales o con el refuerzo de la lucha contra la brecha salarial que es lo que proponen los presupuestos para dos mil diecinueve porque de estas cosas van los presupuestos de dos mil diecinueve y no de lamentos por amores no correspondidos como decía el señor

y la enmienda a la totalidad del partido popular aunque lleva la fecha de registro de veintinueve de noviembre está planteada y anunciada por el propio

el cinco de septiembre porque decidió ligar el rechazo a los presupuestos vascos con el asunto del autogobierno

algún argumento por lo que habría de venir lo que se traduce en ese rechazo presupuestario para dos mil diecinueve que no entiende nadie salvo por la necesidad que tiene el partido popular de vengarse por lo que ocurrió el uno de junio y que además refuerza esa posición estratégica del partido popular tras su congreso en los meses de verano y los socialistas vascos creemos que la escusa del partido popular es vana que su enmienda a la totalidad es una enmienda

no existe un solo euro ni uno solo que avale el argumentario que llevan desplegando los tres últimos meses los parlamentarios y parlamentarias del partido popular y no habrá un solo euro

del marco jurídico en un gobierno en el que estemos los socialistas cosa que por otro lado además saben muy bien los parlamentarios y parlamentarias del partido popular porque

y agradecimiento al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco hace casi siete meses el veintitrés de mayo por la tarde por el apoyo que recibía rajoy del pnv en el congreso todos los medios de comunicación

por lo que era la aprobación de los presupuestos cojan ustedes el medio de comunicación o prensa

entonces estaban encantados de la vida aquel veintitrés de mayo por la tarde cuando firmaron con el partido nacionalista vasco cuando daban la razón al gobierno vasco

bildu y el partido nacionalista vasco en la ponencia para la modificación del autogobierno sobre las bases del autogobierno sobre el preámbulo

sobre esas dos cuestiones sí señor damborenea sí que igual estaba usted despistado pero yo le puedo asegurar que estaba en la misma

que entonces acordaban bildu y el partido nacionalista vasco ese tema del preámbulo y el título preliminar del futuro autogobierno por la mañana

los acuerdos en madrid que daban el apoyo a los presupuestos del señor rajoy así que si en este trámite presupuestario del día de hoy de la enmienda a la totalidad de devolución despejamos el ruido despejamos el atrezzo pues se supone que podríamos encontrar las razones que mueven al grupo parlamentario

de un proyecto presupuestario para el año dos mil diecinueve y esas razones son que se quiera presentar una alternativa real de ingresos y gastos pero es que tampoco va por eso tampoco va muy una alternativa

que en su ideario partidista les vienen bien y que es muy legítimo además porque su enmienda a la totalidad no habla realmente ni propone ninguna alternativa habla de mejoras o de cambios

alternativa popular rigor en el gasto incremento de la inversión y apoyo a pymes y emprendedores para crear empleo estable y de calidad

en el gobierno vasco lo que pretendemos el partido socialista y el partido nacionalista vasco es que eso mismo ni una coma ni un punto más eso mismo y estamos convencidos además de que el proyecto de ley de presupuestos para dos mil diecinueve en su conjunto

es un proyecto que es riguroso en el gasto que incrementa la inversión que apoya a las pymes

que permite además el mantenimiento de los servicios públicos de forma eficaz y eficiente y yo estoy convencida de que ustedes no están en contra de eso no podrían estarlo porque

un contexto económico mucho peor que el que se está planteando ahora para dos mil diecinueve y el grupo popular vasco no tiene alternativa a los presupuestos de dos mil diecinueve porque sabe que la columna sobre la que se vertebra este proyecto presupuestario es la de la estabilidad

la columna vertebral de unas cuentas saneadas y además es algo que el propio partido popular ha venido avalando estos últimos años esa misma columna vertebral además se actualiza incorporando los acuerdos que se han aprobado aquí en esta cámara de estos meses del dos mil dieciocho acuerdos que en muchos casos ha realizado el partido popular en los que se ha sumado

acuerdos por unanimidad acuerdos variados pero también en los que confluía bildu y el partido popular

tampoco es serio ni es riguroso señor damborenea que para justificar lo injustificable se pueda asegurar que este proyecto es

de comentar usted sabe que el partido popular no son quimeras las subidas salariales o el intento de recuperación del nivel adquisitivo de los funcionarios públicos estamos hablando de noventa mil personas

tampoco saben ustedes también que el proyecto de emancipación de los jóvenes ha sido facilitado por el acceso a la primera vivienda como resultado de una ley

la ley de vivienda y sin embargo se convirtió en una realidad que salvó la situación de necesidad de muchas familias y jóvenes en euskadi saben ustedes del compromiso de los socialistas con quienes aún no hemos podido rescatar del colchón de la solidaridad que es esa

es nítido nuestro compromiso en euskadi lo llevamos ejerciendo desde hace

ninguna transferencia ninguna ley de transferencia y saben ustedes que este proyecto de presupuestos es un proyecto fiable en cuanto al cumplimiento

que tenemos contraídas con la estabilidad presupuestaria tanto en europa como en españa

del año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de los presupuestos de aquellos años usted les decía es que se están saltando a la torera el objetivo de estabilidad la ley de estabilidad presupuestaria

que estos proyectos de presupuestos dos mil diecinueve cumplen a rajatabla

en cuanto a los incumplimientos hombre yo les diría realmente ustedes han esperado al día de hoy o al día del registro de la enmienda a la totalidad para exigir el cumplimiento de unos acuerdos presupuestarios que están en vigor desde el uno de enero de dos mil dieciocho y desde el uno de enero de dos mil diecisiete no verdad

pues se sienta en la mesa cuando ve que no se está cumpliendo o va haciendo balance de los cumplimientos pero ustedes se han ido agarrando a ver que

a ver qué ocho motivos encontramos para decirles que no

a la totalidad porque estamos ante un debate ficticio respecto a lo que plantean ustedes porque ese no es el debate no es el debate y ustedes lo saben

se pretende un poco hacer trampa con las inversiones y ustedes saben que el incremento en salud que se da para todo el tema de inversiones

los problemas de índole urbanístico que han tenido para que ciertos equipamientos de salud o equipamientos sanitarios salgan adelante

de la voluntad de los ayuntamientos y de las entidades locales para poner a disposición

que estaban digamos pendientes para esos equipamientos

el gobierno ha afrontado y resuelto con un nuevo decreto que tiene además el consenso de los principales agentes el tema de la justicia gratuita se ha asumido además los medios que declaraba la fiscalía que necesitaba

materiales saben ustedes que se está a la espera de una memoria de necesidades que debe elaborar la fiscalía

ustedes han planteado la supresión de determinadas empresas públicas saben ustedes que es necesario y al menos así se lo ha manifestado el gobierno de mantenimiento de algunas estructuras porque son necesarias para la mejora de la competitividad del sector primario en euskadi en economía social hemos debatido aquí en esta cámara asuntos de economía social además que traía el señor

y la orientación de la política del gobierno respecto a lo que plantean los propios agentes de economía social se ha venido dando en el mismo sentido con otros grupos parlamentarios en cooperación que es algo que ustedes también achacan o que van en contra

y en los países de su entorno en fondos destinados a cooperación y se está doblando el porcentaje del gobierno y que se venía aplicando en los presupuestos

haciendo dejación de competencias en materia de ayudas de emergencias social porque se amplía

a los ayuntamientos lo digo por si luego estamos en el debate y las familias

ha habido bajas tasas de natalidad y que lo previsto en presupuesto responde

que ha sido digamos aprobado en el consejo por unanimidad

por lo tanto no parece muy de recibo acusar de incumplimiento en determinados ámbitos

cuando se ha intentado buscar consensos y planes al menos con una aprobación lo más amplia posible yo entiendo que debe resultarles extraño ese quiebro

aunque no eran los suyos como decía el señor damborenea y no entrar a negociar

proyecto que mejores expectativas presenta y plantea para la sociedad

once mil setecientos ochenta y cuatro millónes un contexto de continuidad en el crecimiento del empleo trece mil quinientos empleos que se pueden obtener mayores más empleo unos presupuestos que además cumplen la normativa de estabilidad presupuestaria la de sostenibilidad financiera

con una apuesta de incremento en la inversión pública de un siete coma cuatro por ciento

que era el tema de la innovación la investigación y en este caso el gobierno a más a más en lugar del cinco por ciento que es el acuerdo que está plasmado por escrito quiere llegar

millónes de euros por tanto los socialistas vascos señor damborenea estamos en absoluto desacuerdo con el planteamiento del partido popular de enfrentar la mejora de las condiciones salariales a noventa mil personas trabajadoras de la administración pública frente a una política fiscal que

en lo que es el planteamiento político ustedes han apoyado una reforma fiscal para dos mil dieciocho afectaba a personas físicas a personas jurídicas a empresas

han apostado por la comunicación en la economía social que llevamos a cabo en el mes de febrero y hoy dan la espantada una vez más planteando una enmienda a la totalidad

que hubiesemos tenido que tener con el partido popular creo que ha sido todo un poco por parte del partido popular el cómo ha planteado su enmienda a la totalidad nada más

señor damborenea le decía al consejero azpiazu yo señor azpiazu sabe que con usted me llevo bien y yo también me llevo

hasta le quiero fíjese lo que pasa que me parece un exceso para una arratiana de cuidado y desde ese afecto que le tengo lo vamos a dejar ahí

ustedes tienen que superar el duelo tienen que dejar de lamerse las heridas de lo que ha pasado en madrid porque

de totalidad de hoy solo se justifica en ese contexto usted apenas tiene razones de naturaleza presupuestaria para

la enmienda de totalidad ha presentado ocho escenarios distintos de los cuales para argumentar ha dicho ocho escenarios distintos para argumentar la enmienda de totalidad de los cuales muy resumidamente madrid uno

seis gure esku dago siete ratificar las bases del acuerdo otra vez autogobierno pnv bildu y ocho liquidación constitución de ocho seis

de naturaleza absolutamente extrapresupuestaria dos son de naturaleza presupuestaria una de ellas es falsa no es cierto

empezó a negociar con eh bildu antes incluso

presupuestos todos los contactos que el gobierno ha tenido con los grupos parlamentarios han sido siempre con todos los grupos parlamentarios hasta

autodescartarse ustedes no han manifestado ninguna voluntad de avanzar en la negociación presupuestaria tanto es así que ustedes pusieron una razón insalvable es decir el acuerdo de bases alcanzado entre pnv y eh bildu para impedir avanzar

la negociación presupuestaria y en este punto lo que le tenemos que decir es lo mismo que le decíamos el año pasado

ellos ponían sobre la mesa razones

de naturaleza extrapresupuestaria y que nosotros no podíamos negociar y además pretendían inhabilitarles a ustedes al partido popular como un posible interlocutor

entonces les decíamos que no íbamos a admitir ningún veto

les vamos a admitir ningún veto y ahora les décimos a ustedes exactamente lo mismo no les vamos a permitir ningún veto

a nosotros no todos los grupos parlamentarios que estamos en esta cámara somos parte del sistema y estamos perfectamente legitimados y elegidos y elegidas todos y cada uno de los parlamentarios que estamos aquí para seguir avanzando y poder llegar a acuerdos

por tanto en ese sentido vamos avanzando por tanto resulta que la única razón de naturaleza presupuestaria serían las inejecuciones presupuestarias dice que estamos destinando a gasto corriente lo que tenía que ir a inversiones

que darpón se ha olvidado de ejecutar las inversiones

la rgi los pensionistas que no es cierto que

ayudarles y que en realidad lo que hemos hecho es

en resumidas cuentas lo que usted planteaba bien empezamos por la inversión no es cierto el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno vasco de inicio ya tenía un incremento del siete coma cuatro por ciento de inversiones además y usted se refería

de este año del dos mil dieciocho aprobado el año pasado y decía qué es lo que está pasando con ese dinero

en cuanto a la previsión de ingresos que había va a haber dos cuestiones uno menor se va a recurrir

de recurrir al endeudamiento y por otra parte se va a poder financiar se ha podido financiar

de euros las inversiones financieramente sostenibles que se han podido hacer porque se han cumplido una serie de recursos dos mil diecisiete

por tanto siete coma cuatro por ciento de incremento en el presupuesto y además también más de cincuenta y cuatro millónes vía remanentes decía usted

vinculando todo usted decía que el gasto corriente ha incrementado bien el capítulo segundo

dos mil ochocientos setenta y cuatro coma seis millónes el ochenta por ciento

el gobierno decida invertir en el contrato programa osakidetza en la salud de las vascas y de los vascos

este año el departamento de salud tiene un incremento de ciento veintidós millónes de euros por tanto evidentemente lo que es algo bueno usted

en algo que no sería bueno aparentemente de cara al discurso político dice en su enmienda a la totalidad que penaliza a los trabajadores del sector privado

montoro acordó con los sindicatos precisamente ese incremento salarial que ahora se está planteando en los presupuestos por tanto muy alejados señor alonso no estarían

de este planteamiento político y presupuestario cuando usted está muy cerca de montoro en la comparecencia en comisión azpiazu les dijo y leo literal los salarios pactados en convenios este año contemplan un incremento del dos coma tres por ciento el total de los vigentes

apunta a un incremento del uno coma seis por ciento frente a un cero coma cinco por ciento en el conjunto del dos mil diecisiete

este panorama salarial que además está condicionado por grandes desigualdades debe ser tenido en cuenta por el sector público y en ese contexto se plantea el incremento

le he dicho ya en qué nos hemos gastado o a qué han ido dirigidos esos excesos o esos incrementos de recaudación ayudas de emergencia social ustedes dicen que no se destina más dinero a ayudas de emergencia social no es así se destinan

precisamente a la parte que complementa y se destina a aquellos ayuntamientos que complementan con sus recursos las ayudas de emergencia social

decía quitamos de conciliación familia e inversión inversión ya se lo he explicado

a la familia en concreto a las ayudas de conciliación en el ejercicio dos mil diecinueve

se incrementa una partida de diecinueve millónes quinientos sesenta mil setecientos noventa y cuatro

pero si usted ha podido leer también la propuesta que está circulando a la que le invitamos que se una que el gobierno vasco ha presentado para mejorar verá

que precisamente se refiere a la eliminación porque nosotros acordamos con ustedes eliminar esta reducción

a lo largo de la legislatura y en esta propuesta está aprovechen la ocasión vamos a hacerlo

conciliación de la vida familiar y laboral básicamente eliminando las reducciones existentes hasta ahora es decir lo que usted pedía vamos a ver en educación

en cada sistema setenta por ciento se destina a la pública y treinta por ciento

desde un presupuesto público línea cuatro y cinco el programa de gobierno tiene incluido hacer un estudio y en el presupuesto del dos mil diecinueve se incluirá la realización de esos estudios informativos vamos a las obras previstas bien cuáles son las razones porque claro ya le he dicho una premisa era falsa las otras son explicables o argumentables aiete osakidetza contaba con el proyecto de ejecución desde el dos mil diecisiete

el uno de julio de los dos coma siete millónes de euros previsto en el dos mil dieciocho solo se ha podido

en octubre por tanto se está realizando ya y se ha presupuestado cuatro millónes en el presupuesto del dos mil diecinueve no se ha podido ejecutar porque los instrumentos de planeamiento municipales han finalizado recientemente pero hay cinco millónes presupuestado en el dos mil diecinueve usted sabe qué complejas son estas obras y qué dificultades podemos encontrar

con los distintos instrumentos y con los distintos problemas en los ámbitos locales zalla

para poder calificarlo como no inundable y usted decía que claro qué hace el gobierno vasco coge todas esas partidas de inversión que no van a inversión y las destina a gasto corriente que ya hemos demostrado que no es así le voy a decir a qué se han destinado todas esas partidas

que eran inversiones y que se han destinado precisamente a inversiones bien vamos a ver las cantidades previstas para estas actuaciones y no ejecutadas están aprovechadas para por ejemplo adelanto en la adquisición de equipamiento

equipamiento correspondiente de la apertura progresiva de eibar unidad de reproducción asistida de araba actualización de angiógrafo en el hospital de donostia reforma de la segunda planta de hospitalización de santa marina

adquisición de angiógrafo retinógrafo para la osi de barakaldo sestao sostenimiento de la red de ascensores por ejemplo

y podría decirle más la retirada de fibrocemento de varias cubiertas del hospital de donostia todas ellas inversiones además y el departamento de salud prevé sesenta y nueve coma siete millónes de euros

por ciento de incremento para inversiones vamos a ver justicia gratuita se lo ha dicho

por intentar responder con distintos datos las listas de espera las listas de espera son también una prioridad del departamento y en el dos mil dieciocho se han habilitado recursos económicos extraordinarios para la mejora de las listas de espera con que suponen treinta y siete coma nueve millónes de euros cuantía contemplada también para el presupuesto

todo el día de hoy para defender todo lo que usted ha hecho

créame que me encantaría poder hacer eso señor alonso

no le lleve a su grupo a no poder aprobar este presupuesto pero si es infinitamente mejor que el del año pasado si es el que ha presentado

se ha ido trabajando ha llegado aquí es que decía no hay nada para empleo pero si tenemos todas las de lehen aukera inserción laboral retorno juvenil planes locales de empleo fondos de acciones reciclaje plan de brechas salarial planes de igualdad plan para trabajadoras

circular la renta de garantía de ingresos para las personas pensionistas la eliminación

nos quedan un día y medio un día entero y unas horas yo creo que

porque que las dos representantes de los grupos que apoyan al gobierno salgan aquí a pedirnos el voto a nosotros es sorprendente al menos señora corcuera nos dice que nos hemos esforzado poco

que el cinco de septiembre ya dijimos que con ese acuerdo de bases con eh bildu nosotros no jugábamos

puedo entender que para usted no sea importante o no sea relevante ese acuerdo

para nosotros es muy importante en cataluña empezaron así así empezaron los nacionalistas catalanes con esos pactos entre ellos al margen de la constitución y al margen del propio estatuto

yo le tendría que hacer otra pregunta que es qué hacen ustedes en ese gobierno

ya sé que fuera del gobierno hace mucho frio y hoy más un grado

ustedes en su día hubo alguien en su grupo que decía que eran flexibles a lo mejor cada vez son más flexibles

y llegan a ser tan flexibles que acaban tumbados de un lado a otro

sabemos para qué estamos y qué defendemos y por supuesto que estábamos encantados de la vida con los presupuestos que aprobamos en madrid pues claro que estamos fíjese si eran tan buenos que ustedes los han votado y mire

que no se les pagan las indemnizaciones pero sin embargo en la privada y en las ikastolas sí

señora gorospe yo también la quiero mucho me dice que no damos razones presupuestarias en fin creo que se ha pasado usted bastante tiempo hablando de las razones presupuestarias que nosotros habíamos dado por lo tanto alguna

pero sí a nosotros también nos llamó antes de aprobar los presupuestos y el gobierno hizo una cosa muy curiosa que es

tú me mandas tu propuesta y a partir de ahí podemos hablar los que mandaron sus propuestas y sobre lo que se ha negociado antes de aprobarse los presupuestos y por eso los presupuestos ya venían como venían y algún representante de bildu en la comisión de hacienda dijo que en fin que estos

y usted estaba conmigo en esa comisión señora gorospe y eso no lo dije yo

si los presupuestos habían cambiado un poco en ese ínterin antes de traerlos aquí oiga para no tener

usted sabe el consejero sabe el gobierno sabe su partido sabe el partido socialista sabe

que complementa ingresos de los vascos sin distinción si son pensionistas o no son pensionistas es hacer

y hacerse trampas en el solitario decir que les voy a subir a unos beneficiarios de la rgi y a otros no porque la subida es genérica la subida es genérica el siete

y por cierto de dónde van a sacar el dinero que no nos lo ha dicho pero nos lo puede explicar

por ciento se le ha olvidado la coletilla sin contar la y

incluye todo y ya sé que la y no la financiamos nosotros con los ingresos de los impuestos

pero esa es una inversión que hace el gobierno vasco en el país vasco y por lo tanto para el dos mil diecinueve el presupuesto de inversión del gobierno vasco el que va

esa es otra ya veremos lo que ejecuta ya veremos lo que ejecuta

lo que este gobierno iba a gestionar de inversiones pero es que lo dice el propio gobierno pero no me hagan trampas con las comparativas sube el siete por ciento sin contar con la y oiga y ustedes en la y cuánto ejecutaban cuánto ejecutaron cuánto van a ejecutar

eso es gasto corriente y los quinientos treinta y cinco millónes de euros de más previstos para el año que viene van ahí al primero al segundo al tercero y al cuarto no solo a osakidetza

y que se puede gestionar mucho mejor por cierto y esperemos que se gestione mucho mejor a partir de ahora y nos dice montoro aprobó los salarios de los funcionarios sí sí montoro llegó a un acuerdo oiga y montero

va a aprobar algo va a tener ley de presupuestos porque lo que se lee por ahí es como que parece que no

me habla de la disposición adicional sexta que están dispuestos a quitarla oiga

quítenla nosotros si propusimos quitarla hace dos años y ahí la mantienen la línea cuatro y cinco están en estudio y pero dejen a ver dejen de engañar a la gente

que no se iba a hacer y además por cierto se aprobó una moción aquí gracias al cambio de voto suyo y del bildu y se acordó que no se haga

bueno con la nueva reforma educativa pues pueden repetir no sé cuantas y arrastrar no sé cuantas asignaturas para pasar de curso

ya vale ya vale de estudiar veinte años estudiando para que llegue de la plaza elíptica a rekalde es mucho estudiar tampoco hay tanta distancia

de los incumplimientos en materia de inversiones de salud y además

y son incapaces de gestionar nos viene ahora diciendo no es que tal y entonces nos lo hemos gastado en otras cosas

todo no eh todo no porque cuando se disminuye el presupuesto inicial en más de doscientos millónes euros es que se han

cuando el presupuesto final es doscientos millónes inferior al inicial es que se han inejecutado doscientos millónes señora gorospe

nos pide el voto a estos presupuestos pero se dirigía a bildu con las propuestas que ustedes les han ofrecido

pero cómo pretende que nosotros le votemos lo que le han ofrecido a bildu si

nosotros no somos tan volubles ni tan flexibles creemos pocas cosas pero las que creemos las defendemos cuando nos parece que son buenas para los ciudadanos las defendemos y no nos importa quedarnos solos defendiendo la educación concertada

no tenemos ningún problema ahora también le digo una cosa como he dicho antes

y más posibilidades tendría el gobierno de hacer todo lo que dice el señor consejero que quiere hacer pero

o con las siglas anteriores a bildu siempre han sido malos para el país y un fracaso tal y como dijo el lehendakari no hace mucho

sí gracias presidenta señor damborenea yo lo que siento es que vuelven ustedes al cuanto peor mejor

hemos estado en la oposición y hemos ejercido una oposición responsable y además constructiva hemos estado y estamos en gobierno

constructiva y además responsable sus razones o la razón de esta enmienda a la totalidad usted lo sabe es únicamente política obedece única y exclusivamente a un afán revanchista

en el gobierno de españa debido a una moción de censura a rajoy que el pnv apoyó en el congreso de los diputados y que permitió la investidura de pedro sánchez

esa es la clave la única razón que les lleva a ustedes a presentar y a defender esta enmienda a la totalidad dice

oiga y ustedes que decidieron y amenazaron con enmendarlos los suyos sus presupuestos

en fin situaciones extrañas se dan en todas partes y para todos señor damborenea

negociador una posición legítima sin duda pero que también es lamentable el argumento del pacto de autogobierno entre bildu y el partido nacionalista vasco

acordaron con el partido nacionalista vasco y el gobierno el veintitrés de dos mil dieciocho por la tarde los presupuestos el apoyo a los presupuestos de rajoy con el pnv y le vuelvo a repetir esa misma mañana se daba el acuerdo entre pnv y bildu con el preámbulo y el título preliminar no me haga así porque una de dos o los medios de comunicación engañan todos

el correo el pnv aprueba el presupuesto a rajoy bildu y pnv regularían el nuevo estatuto cómo se lograría la nacionalidad vasca

la razón aprueban los presupuestos con el apoyo del pnv rajoy ata la legislatura pasa a la ofensiva el pnv dio el sí ayer a las cuentas de montoro mientras pactaba con los abertzales la nacionalidad vasca y el derecho a decidir en el preámbulo del nuevo estatuto

claro y me dice usted a mí el acuerdo este de autogobierno entre bildu y el pnv

si no me preocupa claro que me preocupa ya presentamos en su momento nuestro voto particular lo que me preocupa más todavía es que ustedes por el hecho de unos presupuestos les de lo mismo

no se qué tipo de posición ustedes son los que por la tarde estaban alabando al partido nacionalista vasco porque les apoyaban el presupuesto

y hete aquí que por la mañana habían pactado con bildu señor damborenea un poquito

y de rigor no le importó al partido popular lo que ocurrió aquel veintitrés de mayo por la mañana con el tema del autogobierno y el pacto

le importó y a los hechos me remito la clave de bóveda de este asunto está en la revancha y en la desesperación del partido popular con el cambio del gobierno

el grupo popular vasco a un clavo ardiendo para buscar en realidad

el uno de junio encontraron el del autogobierno algún otro más entre ocho motivos pues algún otro más de peso que ha dado pero realmente ese es su problema que no admiten ni admitirán ni la moción de censura a rajoy cuando salió adelante

como presidente del gobierno del estado ese es su problema y esperemos que en algún momento
sean ustedes capaces de darle la vuelta y entrar a lo que es la política en euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea

acuerdan un día sí y otro también aquí en el parlamento vasco temas sectoriales de estos que se incluyen en el presupuesto de todos los departamentos un día sí y otro también o sea que

el gobierno vasco desde luego lo ha dicho el consejero azpiazu

presupuesto es responsabilidad del gobierno pero nosotros como grupo parlamentario desde luego la negociación la tiene abierta y está abierta

fue antes de que se presentara el presupuesto llamar a todos los grupos parlamentarios para poder presentarles cuál era el escenario

del marco presupuestario cuáles eran los planteamientos que había

para que de esa forma pudieran incorporarse en el presupuesto y no estar limitados

al gobierno vasco y no estar constreñidos por lo que sería el crédito global y las dificultades que podrían tener para llegar a acuerdos posteriormente

no insista en la propuesta que está encima de la mesa es así la subida general tres coma cinco por ciento para el total y para las pensionistas en dos años un doce por ciento siete por ciento este primer año

perciben setecientos treinta y dos euros esta subida que se plantea supondría cincuenta y uno coma sesenta y cinco euros más y

cada uno verá si considera que es mucho o poco la está presupuestada lo que se pretende ejecutar ya desde el año pasado se empezó a hacer ese esfuerzo incluyendo en el presupuesto aquello que efectivamente se considera

le llevaba por la calle de la amargura pero le doy también del tercero y del primero

cero incremento doscientos treinta y tres en el dos mil dieciocho y doscientos treinta y tres millónes en el dos mil diecinueve

pues hemos insistido que consideramos que ha llegado el momento de que las personas que están trabajando en la administración pública vayan recuperando su poder adquisitivo

pero cabe la posibilidad y de ahí el incremento que en el capítulo

casi un cuarenta por ciento del esfuerzo que se hace presupuestario

que veinte años de estudios son muchos años de estudio pero en esta vida hay que tener mucha paciencia

estudiar y que no haga falta por paciencia no va a ser por nuestra parte

es que nos está pidiendo el voto a nosotros a mí me encantaría poder

que lo pudiera hacer el año pasado en el debate desde nuestro grupo parlamentario les decíamos a eh bildu

en la oposición y me encantaría volver a decirles

quieren situarse el año pasado les decíamos que más allá de la crítica y de la confrontación política hay todo un mundo político que no se atreven a explorar que se atrevan a explorar les decíamos que hasta ahora nos habían puesto siempre condiciones insalvables y egibar recordaba en una canción

y decía se ha abierto una ventana a la esperanza y nosotros consideramos que estamos en un escenario que es nuevo no se había dado esto antes hau

nos gustaría que este avance no terminara en un frenazo ojalá

aunque vemos con máxima inquietud la actitud de uno de los socios de gobierno que amenaza con volver al ciento cincuenta y cinco dos abstenciones y lamento tener que salir

que tenemos un compromiso firme por parte del gobierno para complementar las pensiones más bajas lamento decir que a pesar de todos los esfuerzos el gobierno está todavía lejos de dar una respuesta satisfactoria a miles de pensionistas

a un plan de empleo de calidad pese a todo no damos la batalla por perdida ahora

y esperamos además por su parte que esto no sea la crónica de una prórroga anunciada lo digo

dijo que no consideraba la prórroga una opción dramática y cito

con una evolución positiva de la economía y un incremento de la recaudación en esta euskadi con una economía positiva y un incremento de la recaudación como usted dice señor urkullu viven miles de pensionistas que cobran trescientos o cuatrocientos euros pensionistas pobres

la apuesta de euskal herria bildu ha sido una apuesta muy clara desde el principio ninguna pensión por debajo de los ochocientos cincuenta y ocho euros

y ustedes lo saben estudiar la situación de los colectivos con más necesidades para detectar las situaciones más acuciantes

incorporándolos al derecho con compromiso de hacerlo duintzeko bide bat da y empleo de calidad que pasa entre otras cosas

mediante los planes que proponemos porque ello ni euskal herria bildu

el bienestar por eso tenemos que corregir este presupuesto irailean politika orokorreko plenoan esan nuen bezala ezin ditugulako herritarrak resignaziora kondenatu esperantzara begira jarri behar ditugulako kondenatzekotan inor esperantzara kondenatu behar dugulako y es importante y lo dije también en septiembre

de los populismos filofascistas como estamos viendo en buena parte de europa y también en el estado español ez dira herri akordioak izango herritarrei bizkarra ematen bazaie

a este gobierno no le importe la juventud las mujeres o que no le importe

de miles de pensionistas que no llegan a fin de mes euskal herria bildu ha hecho una propuesta concreta factible y todavía hay tiempo de que el gobierno se la tome en serio